universidades y centros de investigación de primer orden representa un amplio abanico de expertos de países europeos y asociados están incorporados entre ellos

eso significa por un lado que tenemos empresas y centros de conocimiento suficiente como para incorporarse al liderazgo de la alimentación europea y por otro que dispondremos del privilegio de poder seguir muy de cerca las innovaciones y sugerencias que surjan del consorcio premiado

se une al hecho de haber incluido dentro de la estrategia ris tres y en su ámbito de prioridad de biociencias a la alimentación como un nicho de oportunidad

se encuentra entre las prioridades de su departamento para esta legislatura gure taldean ere uste dugu lehentasun politikoa eman behar zaiola elikagintzari

y aunque la alimentación siempre ha sido importante creo recordar que fue garcía márquez quien dijo que la comida es tan importante como el amor solo que este último no alimenta ha pasado a tener una relevancia fundamental

de los conocimientos vinculados a la producción de alimentos tanto desde la producción primaria como desde las sucesivas transformaciones como

nuevo conocimiento vinculado a los nuevos alimentos y sobre todo de los nuevos conocimientos

a la relación entre salud y alimentación por todo ello la unión europea ha colocado en el frontispicio de sus prioridades estratégicas para el próximo quinquenio

en qué plazo tiene previsto su departamento presentar el plan esstratégico gastroalimentario

en qué medida ese futuro plan estará alineado con los planes que pueda elaborar la ue a través del consorcio ganador de la convocatoria

porque esos productos sean de cercanía y sostenibles y además tenemos que considerar el impacto ambiental que supone toda la actividad de la agroalimentación si además

la población está envejecida estancada necesita o está demandando nuevos productos y nuevas formas de hacer más sostenibles más saludables en estos momentos

debemos considerarlas como algo realmente novedoso y que genera

en euskadi estamos comprometidos y estamos dispuestos además a trabajar con todo el sector agroalimetario con toda la cadena de valor de forma que

distribuyamos y consumamos todas las personas que vivimos en euskadi sea de la mejor manera posible lo más sostenible posible además en el marco europeo como usted decía en la iniciativa eit food hemos conseguido que dos intervinientes un centro tecnológico azti y una empresa

estén trabajando de forma vamos a decir muy integrada y muy participativa

la innovación el emprendimiento y la formación y el siguiente paso desde el departamento va a ser considerar el plan gastroalimentario como algo que tenemos que poner en marcha en un plazo breve de tiempo incrementando la producción de alimentos en euskadi

desarrollar además un territorio sostenible produciendo productos sostenibles y saludables y estructurando y aunando diferentes iniciativas que se están poniendo

vamos a tener un encuentro con todo el sector desde la parte más de producción hasta el último de gastronomía para incorporar

distintas observaciones que se hagan por parte de todos los agentes de la cadena de valor de tal forma que tengamos ya un plan estructurado

antes de este mismo verano de dos mil diecisiete eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako bigarren puntua galdera iker casanova

no trate de hacernos comulgar con ruedas de molino ha subido treinta y siete altos cargos en el organigrama de su gobierno y además usted en una de las primeras entrevistas que concedió

aparición de tres nuevas consejerías no iba a suponer una proliferación de altos cargos porque efectivamente

ya existían aunque estuvieran sumidos en macroconsejerias por tanto

lo que dijo ha motivado una inflación de la estructura orgánica del gobierno y lo ha hecho además por una simple razón por las necesidades partidistas de su acuerdo con el partido socialista

no está diseñada para responder a las necesidades de las personas de este país sino a las necesidades de su acuerdo de gobierno por eso ha creado un departamento de trabajo

sin presupuesto y como al partido socialista solo le va a corresponder gestionar el cuatro por ciento del presupuesto de este país lo que sí ha sido generoso

no para cumplir una función al servicio de la ciudadanía sino para cumplir las necesidades de su acuerdo a usted le preguntaban cuántos pelos se ha dejado en la gatera

y respondía yo diría que ninguno yo le formulo la pregunta de otra manera cuántos cargos

ninguno es decir ustedes mantienen los altos cargos que tenían en la anterior legislatura y les otorgan al partido socialista

por tanto hay que saber con la que está cayendo a raíz de la crisis económica de la proliferación de casos de corrupción con el descrédito de la política con el descrédito de lo público y de lo colectivo en el que estamos viviendo en los últimos años hay que ser extremadamente cuidadoso con estas cuestiones y nos parece un auténtico

de forma permanente que se apriete el cinturón y se le está respondiendo en términos presupuestarios que no hay dinero

que la creación de nuevos altos cargos por tanto me parece que no es demagogia sino responsabilidad denunciar este tipo de mala praxis política que constituye todo un

porque hay algunos muchos que quieren utilizar todo esto en beneficio propio sobre todo desde la derecha

para impulsar la privatización de todo incluso de la toma de decisiones

tenemos que ser extremadamente cuidadosos y predicar con el ejemplo la estructura de este gobierno no responde a las necesidades de las personas responde a las necesidades de su pacto

al partido socialista pero las facturas del partido nacionalista por favor que se las paguen ustedes y no se las remitan a la ciudadanía vía presupuestos que bastante tienen los ciudadanos y ciudadanas

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor casanova después del tótum revolútum vayamos al grano eta

bigarren egiturarik txikiena osatu dugu el gobierno anterior fue

el de menor estructura en treinta años ahora hemos decidido conscientemente conformar un gobierno con once departamentos adecuado a los retos y necesidades que afrontamos

con menos cargos públicos en treinta años hemos adquirido el compromiso de dirigir más personal público gestionar más presupuesto y lo haremos con transparencia

eskerrik asko en un momento en el que

los presupuestos tendrán que ser particularmente ajustados y sin holgura en el que su consejero de vivienda dice no contar con los recursos suficientes para hacer las políticas que querría

no se incrementa lo que debe escusados en la sostenibilidad del sistema

el que más altos cargos ha tenido en los últimos seis años eskerrik asko zabala andrea lehendakari jauna zurea da hitza

el gobierno que más altos cargos ha tenido en los últimos seis años

el gobierno anterior fue el que menos cargos ha tenido en treinta años y el actual es el segundo menor el segundo menor es cierto que los presupuestos son ajustados pero lo son especialmente para los gastos de estructura interna el presupuesto ha crecido un uno coma dos por ciento

un cero coma dos por ciento la prioridad son las políticas sociales y están garantizadas en los presupuestos como he dicho en la primera intervención

los servicios esenciales cuentan con más recursos económicos que el año anterior la pasada legislatura hicimos un esfuerzo ímprobo de contención

para gestionar y para afrontar los retos de país que tenemos hemos definido una estructura con doscientos cincuenta cargos para dirigir y coordinar once departamentos con once mil millónes de presupuesto y setenta mil trabajadoras y trabajadores es la estructura necesaria y le diré

en treinta años el gobierno anterior y este han tenido el menor número de directivos públicos

con mayor presupuesto el gobierno con la planificación más completa necesitamos esta estructura para responder a todas las necesidades incluidas

requeridas por este parlamento al gobierno durante la pasada legislatura comparecencias seiscientos quince

doscientos siete interpelaciones quinientos ochenta preguntas

proposiciones de ley o no de ley novecientos cincuenta y seis solicitudes de información

requeridas por este parlamento la pasada legislatura y en esta en menos de cien días llevamos ya seiscientos cincuenta y nueve iniciativas requeridas al gobierno insisto este es el gobierno con más presupuestos compromisos a gestionar

por lo tanto la estructura es necesaria adecuada y ajustada eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna zabala andrea zurea da hitza

de la dimensión de sus decisiones sus decisiones a veces su consejero de economía su gobierno

en intentar hacernos ver que todo está determinado

y que no tienen margen para hacer otras cosas pero no es cierto porque sí hay margen

señalando que el gasto social para ustedes no ha sido una de sus prioridades lo vamos a hacer con la política fiscal demostrando cómo no quieren hacer que pague más el que más tiene y lo vamos a hacer hoy denunciando que mientras no encuentran dinero para políticas de vivienda de educación salud o para garantizar un ingreso a los que peor lo están pasando sí que encuentran ese dinero para aumentar altos cargos y asesores

ehuneko hamazazpi gehiago esto representa dos millónes cuatrocientos mil euros de gasto para el bolsillo de la ciudadanía dos millónes cuatrocientos mil diru hori no se gasta en cosas más útiles

social más allá de esas cifras sí quería hacer una correlación cada asesor o alto cargo equivale a ciento cinco familias

cada asesor o alto cargo equivale a la beca de comedor

anual de novecientos veintiocho personas cada asesor o alto cargo equivale a la factura de la luz de sesenta y dos hogares

urkullu jauna de verdad que un gobierno que dice no tener dinero para prestaciones sociales para invertir en políticas de vivienda

resulta que sí lo encuentra para aumentar el número de altos cargos no podemos dejar de recordar que mientras que el gasto

el de asesores y altos cargos es el mayor en los últimos seis años hoy
señor urkullu no he venido simplemente a afearle ese incremento isiltasuna mesedez

queremos señalarle una cuestión de coherencia irrebatible en los últimos meses su consejero de economía decía que aspiraba a contar con el apoyo de nuestro grupo

le hemos señalado tres requisitos uno priorización del gasto social y creación de empleo dos una reforma integral de la fiscalidad y tres ejemplo de austeridad hoy usted ha echado balones fuera con datos etcétera

pero son ustedes los que descartan a nuestro partido isiltasuna y a las fuerzas progresistas cuando
inflan la contratación de asesores y altos cargos mientras

pero mucho pero mucho las cifras mucho qué es lo que no entiende cuando digo que el presupuesto se ha incrementado en un uno coma dos por ciento y el gasto para actos directivos o para personal directivo el cero coma dos por ciento en el presupuesto

en el proyecto de presupuestos de este gobierno supone el setenta y seis por ciento lo más que no ha habido o que haya habido nunca en un presupuesto

para este gobierno es más prioritario que comparativamente cualquier gasto social en un gobierno municipal de podemos ezer baino lehen

en nuestra gestión en el pasado hemos demostrado rigor y responsabilidad también en el gasto público y puedo asegurar a la ciudadanía vasca

adecuada a los retos del país que afrontamos comprometida con lo que es la dirección ejecutiva y comprometida también con las demandas que este parlamento le requiere para eso es la estructura adecuada eskerrik asko

gracias presidenta lehendakari jauna buenos días egun on denoi señor consejero el pasado

diversos datos respecto al sector turístico incluso alababan el hecho de que hubiese un dato histórico de record anual cifraban las entradas de visitantes

y se sobrepasaban los siete millónes de pernoctaciones pero al mismo tiempo que se daban estos datos positivos aparecía también una noticia

además producía algunas dudas sobre la evolución del turismo en euskadi por un lado la encuesta realizada por frontur del

señalaba que se había producido un descenso de entradas cifrado en el doce por ciento

de ocupación hotelera que además se utilizaba en comparecencias públicas

esto suponía un incremento del once coma uno por ciento el eustat sobre el mismo tema cifraba el incremento de entradas de turistas en euskadi

en los datos en muchos casos excesivamente dispares y esto dificulta por no decir que impide a los agentes del

realizar un análisis serio tener un diagnóstico fiable respecto a lo que ocurre en el sector turístico y por lo tanto plantear también o tomar medidas y decisiones adecuadas a lo que está ocurriendo en ese sector y al mismo tiempo implantar luego ya políticas también oportunas y adecuadas ante esas necesidades

la combinación de diversos factores es lo que produce estos datos tan dispares temas como el uso de diversas metodologías acudir a diversas fuentes o incluso una escasa adecuación de algunos

la realidad actual son el detonante de esos datos tan diferentes datos incluso antagónicos que pueden llegar a confundir tanto a los agentes del sector

sobre lo que está ocurriendo en el sector turístico y por lo tanto hace casi imposible plantear y tomar decisiones estratégicas al respecto consejero desde el grupo socialista queríamos una valoración suya qué ocurre con estos datos y por eso le preguntábamos qué medidas van a adoptar usted y su departamento para contar con una serie de datos que sean la base de un diagnóstico fiable y luego poder así tomar las decisiones oportunas ante las necesidades que plantea el sector turístico un sector que cada vez tiene más influencia en la economía vasca y están ustedes a punto de hacer un plan director de turismo

se requiere un diagnóstico claro y fiable muchas gracias

efectivamente las estadísticas del cierre de dos mil dieciséis

han evidenciado alguna discrepancia en los datos y eso como señalaba usted por decirlo de una manera suave puesto que efectivamente cuando los datos lo que expresan es una discrepancia

que hay un descenso del doce por ciento del volumen de turistas extranjeros en euskadi mientras que los datos de la encuesta de ocupación hotelera

un aumento del once por ciento decía discrepancia es la manera más generosa de referirse a esa

tanto la encuesta frontur como la encuesta de ocupación hotelera está elaborada por el mismo instituto por el instituto nacional

y me pregunta usted cuál de las dos ofrece una mayor concreción sobre el número de turistas extranjeros en euskadi obviamente como consejero vasco de turismo quiero decir que el certero es aquel que nos da una subida y no el que nos da un descenso es lo natural pero además es que en este caso es la verdad en primer lugar se refería usted a ello probablemente un cambio de metodología o una metodología diferente es lo que explica estas discrepancias en primer lugar decía la encuesta frontur ha sufrido un cambio en la metodología porque durante el año dos mil quince

de estudios turísticos mientras que en dos mil dieciséis ya se ha hecho responsable de esa encuesta el instituto nacional de estadística y no solamente ha cambiado el titular que elabora la encuesta sino que ha cambiado la metodología sobre todo en la selección muestral por lo tanto hay que coger con cautela la comparación de los datos de dos mil quince dos mil dieciséis será más atinado probablemente el resultado para el año dos mil diecisiete en la comparación de dos mil dieciséis dos mil diecisiete con una metodología homogénea pero lo más relevante en este caso es identificar que ambas encuestas miden cosas distintas aunque se acabe hablando de la entrada de turistas

lo que hace es una encuesta a los turistas en función de las entradas que se producen

tanto por tierra mar o aire analizando los datos de puertos de aeropuertos y

que se realizan por carretera en los puntos fronterizos y esa encuesta lo que pregunta es por el destino principal si una persona dice

y por lo tanto para esta encuesta no cuenta como una entrada de turista extranjero en euskadi en el caso de la encuesta de ocupación hotelera

y por lo tanto si alguien de origen extranjero pernocta en un establecimiento hotelero en euskadi cuenta como turista extranjero independientemente de cuánto tiempo pase

en otros lugares por todo ello el dato de la encuesta de establecimientos hoteleros es mucho más preciso

receptores del eustat que ofrece unos resultados similares es por todo ello por lo que decía que

subió en euskadi este tipo de discrepancias se producen de forma más frecuente de lo que deberían debido a la heterogeneidad de fuentes con metodologías diferentes y que miden cosas distintas

para la toma de decisiones una de las tareas fundamentales de mi departamento como ya anuncié en la comparecencia en comisión es precisamente

consejeros señorías yo hoy no le voy a regalar los oídos ya imagino que tiene mucha gente que lo hace a diario

es dolorosa y que desmiente también esa visión idílica que nos quieren trasladar del gobierno sobre lo que es euskadi vamos a hablar un poco de educación en relación también con

supongo plantear un modelo diferente esto me lo contará usted ahora pero le tengo que recordar cómo vamos y cuál ha sido el fracaso del modelo que tenemos ahora y qué ha pasado en las evaluaciones

en ciencias tenemos tres comunidades autónomas nada más que están por detrás de nosotros que son canarias extremadura y andalucía el peor resultado de nuestra historia

los últimos en matemáticas nos ocurre algo parecido estamos muy por debajo de la media hemos retrocedido y el alumno vasco de cuarto

ocurre lo mismo también en matemáticas tenemos un problema también de equidad en nuestro sistema

mañana no va a poder competir lo sabe usted sin embargo estamos también a la cola en el conocimiento de lenguas extranjeras este es un problema de equidad

que no disponen de recursos económicos suficientes tenemos que dar una vuelta al modelo educativo en euskadi señor lehendakari y tomar esto verdaderamente como la principal preocupación y la gran

sigue el mismo equipo la misma política se comete también la torpeza añadida de criticar o de echar la culpa a los profesores no parece haber por su parte una reacción reacción que le pedimos a usted y que asuma el mando y que tome la dirección y que lo tome como una cuestión también muy personal

en euskadi por tanto si usted va a traer una nueva ley cree que esto lo va a arreglar cree que el cambio de modelo necesita de esa reforma legal cuál es su reacción qué plan de choque

a discutir la metodología del informe pisa cuestión que está también a debate

y fui el primero en plantear una reflexión autocrítica en la necesidad de analizar la cuestión en profundidad en solicitar medidas de mejora y en darlas a conocer ante este parlamento ha planteado también en la justificación malestar generado entre la comunidad educativa

hemos compartido diagnóstico con la comunidad hemos planteado la necesidad de consensuar nuevas medidas la comunidad sabe aquilatar lo que este informe

y desde luego el sentimiento no es de malestar es de voluntad de trabajar para seguir mejorando

gran preocupación en la sociedad vasca pues también se lo acepto

y le reconozco que me gustaría incluso que fuera mayor y sobre todo

de hecho planteé en el debate de investidura la educación como uno de los retos de país no oculto los problemas y estoy dispuesto a compartir

constructivo ahora bien mal empezamos si hablamos de pésimos resultados

educativo vasco no me habrá escuchado a mí descalificar así el sistema educativo español y los resultados aquí son mejores los del sistema educativo

y todo lo resultante al final de todo lo que es el periodo de estudios

y siempre han adolecido de falta de consenso el valor diferencial de la educación en euskadi donde por cierto en euskadi

inglés en el estado español el valor diferencial de la educación en euskadi es el consenso con la comunidad educativa el criterio de nuestro gobierno será

mantener la equidad y la universalidad y también avanzar en la excelencia eskerrik asko

estamos mejor que el resto de españa no estamos mejor si casi le iba a decir que copiara usted como los malos estudiantes copia a los de burgos a los de castilla y león sacan mucha mejor nota

un problema del modelo y una palabra que es dura porque hay que escuchar que es fracaso estamos fracasando somos los que más dinero dedicamos a educación los que más capacidad económica tenemos y por tanto somos los que estamos obligados también a ir por delante a estar en la excelencia pero usted sigue diciendo que estamos

de los marcos legislativos nacionales que digo yo que son los mismos en todos los lugares de españa pero con el mismo marco nosotros tenemos peor resultado

a mí me suena también cuando habla usted del pacto y el consenso pues lo del gobernante que cuando va todo bien

lo compartimos entre todos a ver si encontramos una solución yo creo que esa no es un buen comportamiento por parte

dice que van a traer una nueva ley o que se va a hacer y anuncian que va a ser a finales del año dos mil diecinueve oiga si esto es tan importante cómo presentan un calendario donde dicen que educación queda para finales del dos mil diecinueve se lo digo de verdad

y traigan su anteproyecto su proyecto su borrador de ley de educación

cambie el calendario y ponga la educación por delante de todo lo demás porque es la prioridad que la sociedad vasca necesita eskerrik asko alonso jauna lehendakari jauna zurea da hitza

ha creado un sistema de enseñanza del que debemos sentirnos orgullosos centros profesorado familias comparten con la administración la visión de un sistema que debe seguir generando un compromiso compartido y aplicando medidas de mejora continua y esto es lo que estamos diciendo una y otra vez liderazgo mire el gobierno actúa en menos de cien días la consejera ha comparecido aquí en tres ocasiones anteayer presentó un presupuesto que crece el dos por ciento con inversiones y una nueva oferta pública de empleo

una nueva comparecencia para detallar las medidas planteadas para seguir mejorando los resultados de nuestro sistema educativo y le recuerdo el número de personas tituladas con título grado universitario en comparación con el resto del estado

a las demandas de la propia comunidad educativa las que se han presentado o se van a presentar y se trata de avanzar en tres objetivos estratégicos el aula

profesorado ante el desafío de educar en un mundo en una permanente transformación nunca nos hemos conformado y afrontamos el reto como una oportunidad de mejora continua euskadi cuenta con un buen sistema educativo construido en comunidad

desde el consenso un consenso que se consigue con realismo con verdad con responsabilidad y con lealtad eskerrik asko

quiero saludar y agradecer a los miembros de la asociación de víctimas y familiares del tres de marzo no solo su trabajo incansable sino su presencia hoy aquí

no debemos olvidar porque el olvido supone el final decía benedetti

ni sobre nada y sí es la forma velada de burlarse de la historia no olvida quien finge olvido sino quien puede olvidar

olvidar por eso es el pueblo el que no olvida lo ocurrido no podemos olvidar que cuarenta y uno años después los responsables de la masacre del tres de marzo y de tantos atentados contra las libertades de las personas

y le demanda que asuma la normativa internacional sobre derechos humanos y en consecuencia proceda a investigar aquellos terribles hechos de modo que se establezcan las responsabilidades

eta inolako bazterkeria eta mailaketarik gabe adostu zen hoy las víctimas del tres de marzo se consideran víctimas de una cruel ejecución

pero con una decisión política detrás y por ello precisamente la reparación también va a ser política por eso se acordó instar al gobierno vasco a que de conformidad con sus facultades y competencias continúe materializando el derecho de estas víctimas en los términos planteados

al gobierno español por su parte se dijo que otorgue a las víctimas del tres de marzo de mil novecientos setenta y seis el reconocimiento y la reparación que les niega y les corresponde

cantaba hace cuarenta años que les perseguirán nuestras memorias hoy también décimos

porque no vamos a parar hasta que la verdad la justicia y la reparación sean una realidad eta hori da zuekin egin nahi duguna urkullu jauna eta horregatik

y compromiso del gobierno vasco con el reconocimiento a los derechos de las víctimas del tres de marzo ha quedado patente y ha sido permanente reitero

la asociación tres de marzo recibió el máximo reconocimiento de nuestro país en el día internacional de los derechos humanos el premio rené cassin en nombre de la plataforma de apoyo a la querella

presentado el doce de junio pasado las víctimas del tres de marzo tienen un tratamiento diferencial en un apartado específico como también se dice en el punto cuatro de la proposición
no de ley el gobierno vasco continúa materializando los derechos de estas víctimas y así va a seguir siendo eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

gracias señora presidenta buenos días a todos buenos días señor lehendakari buenos días también a vecinos

esta interpelación señor lehendakari hace una semana

en el centro del mismo colocaba la necesidad de un nuevo estatus y la reclamación de nuevas competencias en ese programa uno de los

por supuesto señor urkullu nosotros respetamos que usted reclame un nuevo estatus que reclame más competencias que reclame más autogobierno

de los vascos en este parlamento nosotros debemos pedirle un mejor autogobierno porque no todo está o no todo debiera estar al menos en pedir

nuestro autogobierno es la envidia de europa la cuestión es en ejercer bien ese autogobierno en sacarle todas las potencialidades

y desde luego en la asignatura de la reclamación y del lamento su gobierno y usted sacan muy buenas notas diría que sobresaliente en el ejercicio de las competencias de las que sí disponen en ese la nota baja bastante

empeño en preguntarle de forma recurrente por lo mismo pero es que cuestiones que a lo mejor para usted y su gobierno no son trascendentes sin embargo para los ciudadanos ciudadanos como los que están sentados ahí arriba sí que lo son

para su comunicación para su trabajo para su vida diaria la razón

es que hay infraestructuras importantes en campaña o para ser reclamadas cuando gobiernos de un color diferente

pero que son olvidadas en un cajón cuando se está ejerciendo ese gobierno y le decía lo del empeño porque la pasada legislatura le pregunté por el mismo asunto y la razón era que si apostamos por la sostenibilidad por el progreso por la innovación por la vertebración del territorio

es necesario complementar las infraestructuras ferroviarias del metro de bilbao y concretamente las líneas cuatro y cinco le preguntaba entonces si existía un compromiso por las personas si existía un compromiso por ese transporte sostenible y con la movilidad

y su reflejo en compromisos presupuestarios hay una gran distancia usted ha manifestado literalmente somos conscientes de que unas buenas infraestructuras de transporte son básicas para el crecimiento económico la mejora de la calidad de vida y la vertebración territorial de euskadi contribuyen también a avanzar en desarrollo económico urbano

pero lo cierto lo cierto es que el retraso que algunas infraestructuras llevan en euskadi es más que considerable cuando se trata de reclamar inversiones

poco ha importado que años atrás hubiera dificultades presupuestarias que estuviesemos en época de estrecheces económicas a pesar de ello eran constantes la reclamaciones

si no se acometían se decía que no existía compromiso con euskadi bueno se ha llegado a decir que incluso había más compromiso con galicia porque el presidente

sin embargo precisamente lo que vale para el gobierno de españa

cómo va a ir la recaudación a si hay o no hay disponibilidad presupuestaria para acometer unas infraestructuras necesarias prometidas

mucho tiempo así esas obras su retraso es más que considerable todavía no hemos culminado la línea tres una línea que ha causado múltiples molestias a los vecinos y pérdidas a los comerciantes una línea que debiera haber estado en el año dos mil doce

por fin se va a inaugurar cinco años más tarde se dijo en su día que cuando se culminasen las obras de la línea tres se comenzarían las obras de la línea cuatro y de la línea cinco es más

le trasladó eso mismo que tras finalizar la línea tres habría que hablar con la diputación

que estaba más avanzado en todas sus fases previas por su parte en el programa de la legislatura dos mil doce dos mil dieciséis recogía como uno de los compromisos el desarrollo de las líneas cuatro y cinco del metro qué se hizo en la anterior legislatura más bien poco o nada en esto usted

concretamente en la parte referida a transporte y movilidad sostenible en la iniciativa doce punto cuatro punto seis hablan de diseño y planificación de las líneas cuatro y cinco del metro también en el acuerdo de gobierno

culminar definitivamente la línea tres del metro que prácticamente está culminada

y yo le pregunto pero no estaban ya planificadas no se llevan exigiendo y prometiendo desde el año dos mil once

no estaban perfectamente hechos todos los estudios previos cuáles son los que quedan por hacer la línea cuatro supondría

pero esa línea no avanza más allá del papel porque hay que señalar que recién iniciada la legislatura con relación a la línea cuatro y confirmado por su propio gobierno solo existe la adjudicación para la redacción del proyecto constructivo en la primera fase tramo matiko moyua

no hay convenio entre diputación y gobierno vasco no hay financiación ni plazos de ejecución es decir no se sabe ni por aproximación las fechas para el inicio y finalización de la obra y lo mismo sucede con la línea se ha puesto de manifiesto que no es una prioridad en esta legislatura y que incluso se sopesa revisar el proyecto con todo lo que ello implica de nuevos retrasos por tanto

como poco por ello los vecinos de galdakao no van a ver llegar el metro en el mejor de los casos hasta dos mil veintiséis siendo muy optimistas

que durante su mandato es decir hasta dos mil diecinueve no se iban a hacer las obras usted lo ha fiado todavía más tarde ha sido ratificado

de nada es decir que lo que se demandaba en el año dos mil once cuando el partido nacionalista reclamaba que en el siguiente presupuesto en el año dos mil doce

para el inicio de las obras es decir diez años más tarde ni tan siquiera los vecinos de galdakao van a ver la primera piedra

por su partido en el año dos mil once no hay que olvidar que con respecto al proyecto de galdakao ya desde el dos mil tres documentos

ferroviario demandaban que se actuase en la movilidad de galdakao

por distintas vicisitudes y tesituras primero tenía dos paradas luego se añadió la de bengoetxe después la del hospital de galdakao

esta última estación como digo está descartada a pesar de que conectaría

un año más tarde no sabemos ni cuándo va a comenzar usted hablaba y siempre habla del compromiso con las personas bien pues ya le hablaba

pueden estar afectadas los vecinos de galdakao

personas que van todos los días al hospital de galdakao están afectados por esta infraestructura

ustedes hablan mucho de escuchar la voz de la ciudadanía vasca de dejar hablar a la ciudadanía vasca

los vecinos de galdakao han hablado han recogido cuarenta mil firmas para que se inicie la obra

se han manifestado en numerosas ocasiones van a ser atendidas esas reclamaciones

por parte de su gobierno de que esas infraestructuras tantas veces prometidas que aparecen en todas las campañas electorales van a pasar del papel al suelo a la obra y van a poder ver

de cuándo van a poder disponer de un medio de transporte imprescindible como le digo

para su trabajo y para que por fin vean cumplida una reclamación tantas veces prometida y tantas veces retrasada

eta gainera zentzu horretan garraioari buruzko planifikazioa egingo da pero cuando hablamos de un sistema de transporte tenemos que hablar de un sistema de transporte integral e integrado las líneas cuatro y cinco ni ninguna otra ni la tranviaria que puede cerrar el anillo ni las ampliaciones en gasteiz

debemos considerar todos los modos de transporte para buscar la eficiencia para dar el mejor servicio posible evitar duplicidades que también es importante hacerlo buscar la mejora del servicio a la ciudadanía es decir que las personas que lo van a utilizar todos los días perciban que es el mejor servicio

que esté basado en un servicio inteligente evidentemente en un sistema inteligente que considere la integración tarifaria donde se defina qué modelo vamos a tener qué tarificación qué sistema de pago se va a utilizar que se establezcan las nuevas

ese análisis de demanda cuál es el modo que responde a esas necesidades qué servicios se van a dar y cuál es la infraestructura más adecuada

ejercer bien el autogobierno eso es planificar bien y decidir cómo lo vamos a hacer además en la última reunión de la autoridad del transporte de euskadi se aprobó la constitución de la autoridad de la movilidad de bizkaia qué mejor experiencia

que analizar cómo se encuentra el transporte en su conjunto en el territorio de acuerdo con todos los ayuntamientos y la diputación foral de y analizar cuáles son las necesidades a futuro y qué modo y qué sistema de transporte responde mejor a las necesidades de los ciudadanos porque estamos hablando de eso no de hacer un tranvía o un metro

y tenemos que considerar algo que se hizo con el tranvía aquí en vitoria y lo quiero poner de ejemplo porque cuando se implantó ese sistema se hizo un análisis de la movilidad del conjunto de la capital

una mejora de sus servicios y un análisis que hoy permite tener un mejor sistema de transporte

de hacer las cosas y que debemos tener a futuro por tanto es ahí donde debemos trabajar porque no todos los modos de transporte sirven siempre hay que hacer un análisis

la situación también en la que estamos viviendo no solo económica tenemos que analizar también todas las emisiones de ce o dos que estamos lanzando a la atmosfera y muchos otros aspectos medioambientales que no son menores más allá de todo esto cómo se encuentran las líneas de metro en estos momentos y antes de pasar a las cuatro y cinco sí quiero señalarle y usted lo sabe perfectamente pero quiero recordarle

en el metro de bilbao se puso en marcha la línea uno que ha costado seiscientos catorce millónes de euros la línea dos

ochocientos cincuenta y ocho millónes de euros y además se ha realizado mediante endeudamiento que hace unos años era mucho más posible que en estos momentos la deuda actual viva hoy todavía en el consorcio de transportes de bizkaia

por tanto estamos cerca aunque habremos reducido algo son cuatrocientos cincuenta y dos millónes de euros tenemos que seguir abonando ese crédito ese endeudamiento nada menos que hasta dos mil veintisiete según el plan del consorcio pero además

esa construcción a punto de finalizar son doscientos setenta y nueve millónes de euros sin contar el túnel de artxanda que son otros treinta y seis millónes de euros pero es que hacer la infraestructura no es suficiente como usted bien sabe pero se lo recuerdo hay que poner encima de la infraestructura ferroviaria

el déficit de explotación asociado también hay que considerarlo porque es que el transporte público como usted bien sabe requiere unas inversiones importantes

durante toda su vida porque realmente no se abonan con lo que los usuarios pagamos por su utilización como usted bien dice también las líneas cuatro y cinco se encuentran en el programa de gobierno cuál es su situación a día de hoy

en el dos mil nueve se redactó el estudio básico y en dos mil doce el estudio informativo a finales de dos mil dieciséis comenzó la redacción del proyecto constructivo del tramo matiko moyua con un plazo de redacción hasta el dos mil dieciocho pero es que es

luego no antes de dos mil dieciocho sabremos además cuál es el importe económico que va a tener esa línea porque la redacción del proyecto constructivo requiere ese tiempo en estos momentos además

de matiko hasta rekalde tendríamos que realizar ese estudio y en ningún caso hemos valorado todavía el material móvil en el caso de la línea cinco el proyecto constructivo lo referido a la obra civil está terminado

se está redactando el proyecto de instalaciones es decir catenaria señalización comunicaciones escaleras mecánicas ascensores todo lo requerido además del proyecto constructivo

pero además de todo esto una vez finalizado esta parte del proyecto constructivo como usted bien decía finalizados todos los proyectos hay que sentarse

cuáles son las necesidades presupuestarias cuáles son las posibilidades para hacerle frente y cómo lo vamos a hacer cuál es el esfuerzo presupuestario conjunto que tenemos que hacer en este momento y observar si realmente

la infraestructura que se ha planificado es la mejor y cómo afecta a los servicios actualmente existentes y cómo lo tenemos que modificar de acuerdo con como le decía el ejemplo por ejemplo de vitoria gasteiz el esfuerzo

es y ha sido muy importante y lo va a continuar siendo pero como decía también hay que analizar la movilidad en su conjunto hay que ser

realista y saber con qué dotación presupuestaria contamos todas las administraciones no solo el gobierno vasco y sobre todo

centrarnos es en dar un buen servicio no con qué medio lo damos sino en dar un buen servicio y en responder a esas necesidades que todas las personas usted me hablaba de los que
por ejemplo van al hospital de galdakao cuál es el mejor servicio que se les puede ofrecer y eso es en lo que nos tenemos que centrar eskerrik asko eskerrik asko tapia

gracias de nuevo señora presidenta gracias señora tapia por las explicaciones la verdad es que ya sabía que me las iba a dar usted aunque yo la interpelación

sabía perfectamente que como en este asunto poco pecho puede sacar su gobierno como su intervención no iba a ser de tinte publirreportaje que son las que le suele gustar pues evidentemente no iba a salir a contestar

la verdad es que

decepcionante y preocupante su contestación porque ahora nos hablan de ver si el metro es el mejor transporte

todos hemos compartido que uno de los medios de transporte más sostenibles más ecológicos y desde luego

con el cuidado medioambiental es el metro y tengo que decirle que independientemente que es verdad que hubo menos viajeros el año pasado sin embargo

pero es que también le tengo que decir que tanto en la línea cuatro que va

como los medios de comunicación a galdakao dejan bastante que desear los que existen en este momento dejan bastante que desear

la llegada del metro es algo que se ha prometido en muchísimas ocasiones

para la siguiente legislatura si gobernamos nosotros va a ver metro en la siguiente legislatura y ya no sabemos ni cuándo va haber

han visto cómo eran bajados de una lanzadera cómo primero iban a etxebarri luego ahora ya van a bolueta

porque conectarse con el metro es su mejor medio de transporte luego qué mejor prueba que esa

para los vecinos de galdakao que cogen la lanzadera para después unirse al metro

que hace falta ver la planificación lo que dice la autoridad de la movilidad y

las disponibilidades económicas y presupuestarias bueno esto es nuevo lo de la planificación y la autoridad de la movilidad es

queda mejor que decir que es verdad que estamos en estrechez económica es verdad que muchas obras hay que hacerlas contra deuda pero también es verdad que ni la línea cuatro ni la línea cinco son una prioridad para este gobierno claro eso es duro decir verdad

los vecinos de rekalde de matiko los vecinos de galdakao no son una prioridad para este gobierno no lo son porque todas las cuestiones que usted me ha dicho de planificaciones se podrían haber hecho antes porque determinadas cuestiones que usted ha puesto

se pueden hacer paralelamente es cuestión de voluntad política y es cuestión de compromiso político y económico y ustedes no tienen ninguno de los dos

me podrá hablar ahora de planificación de la autoridad de la movilidad

de ver si realmente les gusta el metro a los vecinos

y se están manifestando continuamente para tener metro digo yo que lo considerarán

de lo que vale cuando hablamos en el gobierno de españa y en cambio

porque ustedes presentaron en el congreso de los diputados urgían al gobierno a que en el plazo no superior de tres meses

y ello a pesar de que a la vez estaban demandando que había que modificar los proyectos porque dos llegadas que antes no era soterradas iban a ser soterradas pero en el plazo de tres meses se tenían que presentar

y ustedes no se comprometen a hacerlo ni en esta legislatura porque primero hay que ver el plan hay que hablar con la autoridad de la movilidad y luego ya si acaso veremos si realizamos

porque no tienen ni voluntad política ni compromiso político ni compromiso económico y claro

y vamos a ver cómo esos plazos no se cumplen de todas formas

cuando habla de publirreportaje y subo yo porque el lehendakari no lo va hacer un poquito de respeto a partir de ahí no confunda

con una infraestructura porque usted está haciendo un discurso tendencioso absolutamente tendencioso porque lo que no está teniendo en cuenta es que el mejor servicio en un determinado momento

un metro puede ser un tranvía puede ser un tren de alta velocidad confunde el servicio con infraestructura dígame cuál es el mejor servicio y veremos cuál es la mejor infraestructura no modifique las cosas cuando hablamos de que tenemos que hacer una planificación evidentemente y la tenemos que hacer no con algo que nos hemos inventado que es la autoridad de movilidad de bizkaia sino con algo que está puesto en marcha precisamente por eso

porque hay que mejorar la situación porque nos estamos duplicando porque en muchas ocasiones esa reducción de los viajeros en el metro es porque tenemos servicios

porque los usuarios son los mismos y se reparten en una y otra infraestructura luego vamos a mejorar el servicio para que ese usuario tenga más frecuencia mejor servicio

que no lo quiere usted ver usted misma pero desde luego es una forma de trabajar

seguir usted me habla de que las personas que viven en galdakao les gusta el metro claro a mí también

habitantes que viven en zumaia pero no es cuestión de gustos además de preguntar si nos gusta a mí también me gusta

qué quiero hacer dónde quiero llegar con qué frecuencias eso es lo que de verdad tenemos que responder y desde luego dejarnos de hacer

a todos y no solo el metro sostenible es sostenible y he dicho un sistema basado en un sistema ferroviario y el ferroviario tiene muchas posibilidades por tanto

de la mejor manera posible planificadas conjuntamente en este caso con la diputación foral de bizkaia como le he dicho

no cuándo vamos a empezar sino dónde están los estudios cuál es la planificación de cada uno de ellos y dónde nos encontramos y a partir de ahí evidentemente habrá que considerar el sistema presupuestario y no vayamos a decir que evidentemente también tenemos que ir a endeudamiento bueno

y en ese afán de realismo vamos a contar la verdad pero íntegra

seguimos desde luego comprometidos con estas infraestructuras y con todas las ferroviarias que van a ser la columna vertebral del transporte público en este país con todas las instituciones y trabajando de forma conjunta con los municipios

esa va a ser la forma de trabajar y creo que es además la que existe en todo el mundo y de la que no nos podemos sustraer y de las necesidades y de un análisis de necesidades debe salir qué infraestructuras tenemos que desarrollar si son carreteras si son vías ferroviarias en qué condiciones
y quién las abona esa es una forma de trabajar de ser eficiente de ser realista y de gestionar el autogobierno eskerrik asko eskerrik asko

que supusieron una grave vulneración de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del estado

verdad justicia y reparación a unas víctimas que cuarenta y uno años después aún están esperando la ciudadanía no olvida nosotras no olvidamos

el parlamento acordó incluir en el calendario legislativo la elaboración

erradicación de la violencia contra las mujeres con el compromiso de priorizar la tramitación previa a su

el martes veintiocho el consejo de gobierno aprobó el programa legislativo de la once legislatura un documento de trabajo que guiará la acción legislativa del gobierno vasco durante los próximos cuatro años entre los veintiocho proyectos de ley propuestos se incluye textual la proposición de ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres

un proceso participativo artículo cinco punto cero de la ley cuatro barra dos mil cinco donde se impulsará la participación activa de expertas de diferentes sectores asociaciones de mujeres y el movimiento feministas entre otras por ello se le pedía a emakunde

y poner en marcha mecanismos de control e interlocución entre el parlamento y emakunde desde elkarrekin podemos en ese mismo pleno adelantamos

reiteramos valoramos muy positivamente el acuerdo alcanzado por toda la cámara y también celebramos la sinergia entre el parlamento y el consejero de gobierno hemos podido ubicar en el lugar de prioridad que le corresponde la necesaria revisión del marco normativo para la prevención

atención protección y reparación de las violencias machistas esa vulneración de derechos cotidiana que sufrimos la mitad de la población además de celebrar el acuerdo también

el enfoque o los paradigmas con los que se realizará el proceso no es un detalle menor no es lo mismo legislar sobre violencias machistas sobre atención a víctimas sobre maltrato doméstico y violencia sexual como se recoge en algunos artículos de la ley

sobre violencia de género en el ámbito doméstico etcétera etcétera tampoco es un detalle menor hablar de la ley integral y que esta

es la que garantiza o al menos más acerca a una visión integral del fenómeno tenemos el desafío de avanzar en la cohesión de una normativa que en la actualidad pudiera estar fermentada o ser insuficiente dos

deben incluir la prevención detección precoz la atención la protección y la reparación y necesariamente la integridad se garantiza con el compromiso

de todos y cada uno de los departamentos y organismos autónomos que conforman el gobierno vasco y de todos los niveles de la administración

los otros dos aspectos de preocupación que señalábamos en ese pleno fueron el cómo y el con quién elaborarán el proyecto de ley

emakunde activará un proceso participativo artículo cinco punto cero de ley cuatro barra dos mil cinco donde se impulsará la participación activa de expertas

asociaciones de mujeres y el movimiento feminista entre otras

sobre la partida especial el martes veintiocho tuvimos oportunidad de ampliar información sobre el presupuesto de emakunde de primera mano a través de la directora del organismo la señora

hacienda y presupuestos en síntesis entendimos que no hay partida especial específica habilitada para este proceso

se agudiza porque sabemos que los procesos para elaborar el proyecto de ley de forma participada son altamente exigentes especializados requieren tiempo

colisione con el marco normativo nacional y autonómico las propuestas de los diferentes actores y agentes de la administración

partidos etcétera que desde sus ámbitos de actuación

se necesitan recursos además de voluntad política la directora del instituto vasco de la mujer el martes también compartió información sobre el espacio de trabajo comisión de seguimiento y el segundo acuerdo interinstitucional para la mejora en atención de mujeres

reconocemos y valoramos enormemente el trabajo de la comisión y el acuerdo interinstitucional sin embargo expresamos y reiteramos nuestras dudas

de un proceso de elaboración de una ley porque como su propio nombre indica está creado y diseñado para ser seguimiento para hacer seguimiento no para elaborar una propuesta de ley puede actualizar los acuerdos interinstitucionales pero consideramos que no es el espacio adecuado para elaborar el marco normativo en el que se desarrollen los acuerdos el mismo martes también se mencionaron los procesos que se vienen desarrollando y que se pretenden realizar en este dos mil diecisiete y que según

serán el marco para la elaboración del proyecto de ley como son realizar el informe de seguimiento y evaluación anual del nivel de cumplimiento de los contenidos del segundo acuerdo interinstitucional para mejorar

consolidar el sistema de recogida de la información en materia de violencia homogéneo para todos los ámbitos y realizar la evaluación sobre el alcance y la eficacia de los programas y servicios dirigidos

de la violencia contra las mujeres promover también programas de intervención preventiva y atención a nuevas formas de manifestaciones de la violencia contra las mujeres trata etcétera

han existido históricamente lo que pasa es que estaban naturalizadas invisibilizadas o justificadas también habló del programa de la onu sobre estándares internacionales de calidad en los servicios esenciales en el ámbito de la violencia contraste e implementación en la enmienda transaccional aprobada el pasado veintitrés de febrero

además de los que resulten del contraste de los estándares internacionales

a violencias pueden nutrir el debate e intercambio que se produzca en el proceso de formulación de una nueva ley serán

compleja y critica y realmente preguntamos consideran qué se puede reducir la elaboración de una ley a los informes de evaluación de servicios de atención

con el ánimo de contribuir a repensar el cómo y con quién llevaremos adelante un proceso que tiene que conducirnos a un marco normativo adecuado para prevenir

cómo será el proceso participativo presupuesto plazos metodología espacio de trabajo y toma de decisiones que implementará emakunde para asegurar

asociaciones de mujeres y personas cualificadas de diferentes sectores durante el proceso de formulación de la ley de violencias machistas eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora arana en primer lugar me va permitir una breve

la normativa internacional de derechos humanos así como el convenio de estambul del consejo de europa instan a los poderes públicos a legislar sobre violencia contra las mujeres y hacerlo reafirmando el vínculo existente entre la desigualdad de mujeres y hombres y la violencia contra las mujeres de hecho reconoce que la realización de iure y de facto

de la prevención de la violencia contra la mujer y que la violencia contra las mujeres es una manifestación del desequilibrio histórico entre las mujeres y el hombre

a las mujeres de su plena emancipación euskadi fue pionera en este enfoque ya que disponemos de la ley cuatro barra dos mil cinco

sobre medidas para promover la igualdad dedica un capítulo específico el séptimo a regular medidas tanto para la investigación la prevención y la formación como para la atención y protección de las víctimas reafirmando así el vínculo existente entre la discriminación de las mujeres y la violencia contra las mujeres

fundamentalmente de la aplicación de dicho capítulo el capítulo séptimo y otras normas derivadas de la legislación estatal en la materia todo ello en coordinación

del acuerdo interinstitucional que usted ha mencionado para la mejora de la atención a las víctimas dicho esto hay que señalar que nuestro objetivo prioritario de erradicar la violencia contra las mujeres tenemos que adecuarnos a los marcos e instrumentos jurídicos internacionales y europeos de derechos humanos principalmente el convenio de estambul a las nuevas leyes de protección a la infancia y la adolescencia

y todo ello con el fin de reforzar y complementar la prevención y la respuesta que estamos ofreciendo ante la violencia contra las mujeres

por el que usted pregunta quiero subrayar que este es un compromiso y un modo de hacer permanente de las instituciones vascas implicadas coordinadas por emakunde el ejemplo es la reunión de junio del año pasado de junio del año dos mil dieciséis de cierre de la pasada legislatura

en esta reunión tomaron parte todos los departamentos implicados del gobierno vasco las diputaciones forales

la fiscalía la judicatura el consejo médico vasco el consejo vasco de la abogacía y el ararteko en la misma se tomó la decisión de elaborar y presentar un tercer acuerdo interinstitucional en el periodo de la actual legislatura con el fin de adecuarnos a los cambios legislativos y las nuevas

amplia experiencia de trabajo participativo basado principalmente en la creación de grupos de trabajo específicos en los marcos de las comisiones de coordinación existentes

centrados en la respuesta a menores hijos e hijas víctimas de violencia contra las mujeres y en la mejora de la respuesta a mujeres víctimas con diversidad funcional en los que se ha contado con personas de diferentes perfiles profesionales

tomando como base esta trayectoria acreditada y con la experiencia con que cuenta emakunde está asegurada a mi modo de ver la apertura de una vía de participación activa y real

como de asociaciones y de personas cualificadas de diferentes sectores de cara a avanzar en el proceso de formulación de la ley para erradicar la violencia contra las mujeres y en este sentido y en relación al proceso participativo contaremos con personas

puedan asesorar sobre la mejor forma de regular la violencia contra las mujeres desde un enfoque global integral y en línea con los tratados y convenios internacionales contaremos también con instituciones públicas competentes en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres

puedan orientar sobre las líneas de actuación y la potencialidad de la cartera de servicios y recursos ya existentes contaremos también con profesionales que intervienen en la prevención en la detección y en la atención a la violencia contra las mujeres

profesional puedan detectar los ámbitos de mejora de los servicios de intervención que sería necesario abordar a través de la regulación contaremos también sí

que trabajan con las víctimas de la violencia que desde la experiencia personal y colectiva puedan poner de manifiesto las necesidades existentes de las víctimas que afrontan la violencia y en ese proceso participativo contaremos también señor arana con asociaciones de mujeres y feministas

puedan hacer llegar las demandas sociales de la ciudadanía en materia de violencia este objetivo tiene su reflejo como usted bien ha dicho en el programa de gobierno en el calendario legislativo y también en la propuesta presupuestaria así contamos con programas diseñados con sus correspondientes partidas presupuestarias para el desarrollo y el seguimiento del sistema de información de los servicios en el ámbito de la violencia en el análisis de datos sobre violencia contra las mujeres el contraste de los estándares internacionales de calidad en los servicios esenciales en el ámbito de violencia contra las mujeres definidos por diversos organismos

por lo tanto todas esas partidas presupuestarias sobre esos conceptos serán los que complementen lo que pueda ser esa partida llamada específica para lo que pueda ser la elaboración

del proceso participativo en la comparecencia que ya ha solicitado ante este parlamento eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna arana andrea zurea da hitza

a la que ha hecho referencia que había departamentos de gobierno fiscalía diputaciones ararteko

el personal sanitario que atiende a estas mujeres dónde estaban las feministas dónde estaban las mujeres se lo pregunto no dudamos que se hayan realizado avances en materia de igualdad y en cuanto a violencias machistas se refiere pero creemos que no es suficiente

no lo es y además como con todo lo que afecta a las mujeres como con todo lo que nos afecta vamos tarde

le hemos oído decir que la igualdad es imprescindible para un desarrollo sostenible en su declaración de buenas intenciones decía que quería

entre hombre y mujeres me resulta poco creíble cuando todavía hay departamentos y organismos autónomos

administrativa de igualdad compuesta por una persona técnica en cumpliendo con el decreto doscientos trece barra dos mil siete de veintisiete de noviembre como es el ivap

le parece esto serio le hemos oído decir que los países más avanzadas en materia de igualdad son también los países económicamente más avanzados

son aquellos que dotan de un buen respaldo social político y económico para conseguirlo y para ello por ejemplo tiene una red de haurreskolas con unos precios asequibles para todas las familias son aquellos que contemplan prestaciones económicas por nacimiento

son aquellos que promueven jornadas laborables flexibles y permisos por nacimiento de hijo o hija que posibiliten el reparto de cuidados y tareas sabe una cosa

fue la influencia directa en la política de las reivindicaciones feministas

y que se comprometa a ofrecer una respuesta integral a las víctimas de la violencia lo que tiene sus propias causas tiene también sus propias soluciones por eso avanzamos como sociedad cuando nos dotamos de leyes para diferenciar y distinguir el problema de la violencia machista porque

entendemos no podremos identificarla tipificarla prevenirla y en definitiva acabar con ella nuestras leyes tienen muchos fallos que debemos evaluar y corregir con propuestas concretas propuestas que sean fruto de la experiencia de la sociedad civil de los y las expertas de la judicatura de la educación de la atención sanitaria y por supuesto de las mujeres

las que se ejercen en el ámbito de la pareja y las que no porque las agresiones sexuales y los asesinatos con violación son violencias machistas

los conocidos o los desconocidos estas son formas de violencia la violencia física

la violencia sexual la violencia por prejuicio hacia la orientación sexual identidad de género o expresión de género la violencia económica la patrimonial la simbólica

obstétrica la violencia laboral la violencia en el ámbito educativo

la violencia política la violencia mediática la violencia femicida y las formas de violencia según el ámbito

doméstica violencia comunitaria y violencia institucional todo esto está muy bien a la sociedad y lo entendemos póngase a ello por favor porque vamos tarde siempre con el tema de las mujeres vamos tarde vamos siglos tarde y también le recomiendo señor

estaría bien que escuchase a toda la sociedad a la hora de hacer esta ley

desigualdad que sufrimos las mujeres durante siglos durante mucho tiempo han sido sordos en ocasiones siguen siéndolo nos preocupa que sigan hablando de la ley para erradicar la violencia contra las mujeres cuando ya hace tiempo que se está debatiendo que el enfoque hay que ponerlo

me preocupa también que hablen de la lacra social cuando hablan de violencia contra las mujeres la violencia machista tiene sus raíces en la propia estructura heteropatriarcal

está en su base estructural ideológica y que las violencias machistas tengan carácter estructural significa que estos actos no se deben a unos rasgos singulares concretos y patológicos de unos individuos por todo esto nos preocupa cómo será el proceso participativo presupuestos

de verdad es importante tener el debate en el parlamento es importante que creemos una comisión paralela donde podamos debatir la terminología porque la terminología nos invisibiliza gracias

señora arana la verdad es que en la segunda intervención más que hablar del proceso participativo por el que me interpelaba me ha dado la sensación que

la participación de los colectivos asociaciones que puedan ser en el proceso del anteproyecto de ley me ha hablado usted en la segunda intervención

en la legislatura pasada en todos los consejos de dirección y tampoco me he fijado en cuantas mujeres había o en cuántos

sino en cuál era el contenido de lo que se trataba y qué era de lo que se defendía señora arana hace usted mención a lo que pueda ser

en este momento en cualquier caso más allá de lo que puedan ser las tesis sobre violencias machistas hacía usted referencia también a lo que puedan ser los propósitos de este gobierno en cuanto a querer ser uno de los países más avanzados no es que

euskadi ya es uno de los países más avanzados en igualdad de género lo que aspiramos es a avanzar un puesto más en esa posición

en cualquier caso la transparencia y la participación es la norma general en este gobierno y también en emakunde y forma parte de nuestra forma de gobernar le cito una línea de trabajo puesta en marcha recientemente para la participación en la definición y en la valoración de los entandares internacionales

en el marco de un programa conjunto global liderado por mujeres y el

emakunde fue invitada a participar en el proyecto como experta en la definición de dichos estándares

se decidió participar en el mismo tanto como entidad donante y como entidad partícipe realizando

con el fin de identificar ámbitos de mejora para llevar a cabo esta autoevaluación señora arana ya se han conformado diferentes grupos de trabajo multidisciplinares

contando con la participación de técnicas de igualdad y asociaciones de mujeres señora arana en este proceso están participando también los diferentes departamentos del gobierno vasco y el resto de instituciones implicadas aunando las visiones de salud las visiones de justicia o las de seguridad las de servicios sociales

y paralelamente a estos procesos de trabajo ya iniciados en el marco del acuerdo interinstitucional independientemente sean hombres o sean mujeres estamos diseñando

cuya definición se está ultimando con el fin de recabar las aportaciones de otras personas expertas procedentes de los ámbitos jurídico universitario

entre otros y para su diseño contamos con una amplia experiencia en procesos de consulta y participación

para la elaboración de la evaluación de la ley vasca para la igualdad u otros anteriores como pueden ser la elaboración del sexto plan para la igualdad o la elaboración en su día de la ley vasca para la igualdad

este objetivo está en el programa de gobierno el calendario legislativo el programa legislativo y en la propuesta presupuestaria también con programas específicos

para aplicar un proceso participativo y específico en el que participen

antes de hablar de madrid en relación a lo que pueda hacer madrid

ustedes siempre intentan soslayar que el debate es primero en euskadi intentan escabullirse de la gran responsabilidad que es primero acordar aquí en ese debate no parecen cómodas

pactar cumplir mire si ustedes van a venir cada quince días tratando de ponerme en un brete ante cuestiones que deben ser debatidas en la ponencia de autogobierno

les remitiré cuantas veces sea necesario a esa responsabilidad de debatir acercar posturas ceder transigir y acordar donde corresponde en el seno de la ponencia tenemos una nueva oportunidad de decidir el nuevo marco jurídico político y institucional acordado entre la mayoría más posible

entzuten ari gara behin eta berriz porque hoy en día la situación de las pensiones

a nivel estatal casi cinco millónes de pensionistas cobran una pensión por debajo del salario mínimo interprofesional es decir el cincuenta y uno por ciento de los pensionistas del estado

siete de cada diez son mujeres y me dirán ya pero en la comunidad autónoma vasca la media de pensión es más alta sí es cierto

es decir un treinta y cinco coma sesenta y siete por ciento del total que cobran una pensión por debajo del salario mínimo interprofesional

estas pensiones son el sustento muchas veces no solo del o de la pensionista sino de los hijos y de las hijas o de familias completas y esto nos preocupa

es prioritaria la vía a un sistema de pensiones propio como parte de un sistema de protección social que haga posible una vida y unas pensiones dignas

hemos dejado claro que más pronto que tarde debemos tener la competencia sobre la gestión económica de la seguridad social sin recortes sin cepillados sobre lo estipulado

hace dos semanas mi compañera eva blanco interpeló a la consejera san josé sobre ello y nos vino a decir

que ella opta por mejorar el actual sistema por apuntalarlo

actual sistema es el sistema español y este sistema hace aguas respecto a la dignidad de las pensiones contestó

nuestra prioridad es que todos los ciudadanos y ciudadanas vascas perciban unas pensiones dignas que les permitan satisfacer sus necesidades vitales ese es nuestro objetivo y en este sentido predicamos con el ejemplo y por eso tenemos establecido sistema

para complementar las pensiones cuando estas no alcanzan para asegurar una vida digna eta honekin ados egon gaitezke guk ere

señora pinedo yo no puedo estar más de acuerdo con lo que usted acaba de plantear en el sentido

cuando dice lo siguiente de cara al objetivo de construir una sociedad avanzada y justa tiene una extraordinaria importancia

esa afirmación la hago mía por supuesto incidiendo sobre todo esto queremos decir que el sistema de pensiones es un pilar fundamental

y que debemos dotar de dignidad a las personas a través de las políticas públicas también compartimos entonces el principio de que los seres humanos se merecen un trato especial y digno que posibilite su desarrollo como personas en este sentido el hombre

no un medio para usos de otros individuos lo que le convertiría en una cosa compartiendo lo fundamental creo que la pregunta se debería plantear desde el reconocimiento de que el gobierno vasco viene realizando en el complemento de las pensiones más bajas a través de la rgi un gran esfuerzo en estos momentos de las sesenta y tres mil novecientos ochenta y tres unidades convivenciales beneficiarias de la rgi

a este colectivo se destinaron el año pasado casi cuarenta y tres millónes de euros y mensualmente se abonan casi seiscientos mil euros a las unidades convivenciales pensionistas

denomina renta básica para la inclusión y protección social es una prestación dirigida a las personas que no dispongan de ingresos procedentes de renta de trabajo y cuyo nivel mensual de ingresos no alcance el importe de la renta básica para inclusión y protección social y sea insuficiente para hacer frente

como a las necesidades básicas como derivados de un proceso de inclusión social y laboral debemos ser conscientes y consecuentes con los datos

las prestaciones de nuestro sistema de garantía de ingresos son lo que más directamente se centran en la población de mayor situación de riesgo un noventa y seis coma seis por ciento del gasto de la rgi de la prestación complementaria en vivienda

en pensiones el ochenta y tres coma dos por ciento y del gasto estatal en desempleo y otras políticas sociales un sesenta y tres coma cuatro por ciento

son precisamente los límites del sistema general de protección del estado los que dan sentido social al sistema de garantía de ingresos de euskadi este aporta un cuarenta y uno coma siete por ciento de los ingresos de la población que se enfrenta a situación de pobreza real esa aportación

del veintitrés coma dos por ciento que corresponde al conjunto de los ingresos procedentes del sistema estatal de protección general desempleo pensiones y otras prestaciones y creo señora pineda que si añadimos el incremento de los treinta millónes de euros

y prestaciones complementarias en vivienda previsto por este gobierno para el ejercicio dos mil diecisiete podemos asegurar

para dotar de dignidad a las pensiones más bajas usted dirá que negarles el incremento del ocho por ciento de la subida del salario mínimo es restar dignidad a estas personas

argumentado el tema ha de ser tratado en lo que tiene que ser la reforma de la renta de garantía de ingresos en el parlamento y de esta reforma

esa normativa dicho esto y aunque usted considere que debemos ir más allá de la solicitud de la competencia de las pensiones creo que al igual que se transfirieron las políticas activas también debemos asumir

el lehendakari ya en un pleno de control como el de hoy recordó que el estatuto contempla que las instituciones vascas

en los términos del estatuto de autonomía dentro del principio de unidad de seguridad social garantizando la solidaridad y suscribiendo convenios con los órganos estatales como se menciona en la disposición transitoria quinta este traspaso puede compatibilizarse a través del concierto económico

asumir la gestión del régimen económico de la seguridad social dentro de su carácter unitario y de respeto al principio de solidaridad todo ello mediante un convenio

además según un estudio del colegio de economistas vascos un sistema vasco de pensiones sería viable y estos profesionales estiman que es necesario recorrer ese camino

de las pensiones sociales contributivas partiendo de la base que el actual modelo de financiación no garantizará en el futuro

es necesaria una reforma global del sistema de cara a adaptarlo a la realidad de euskadi

es ir más allá de los parches con los que se han mantenido a flote el barco desde los diferentes gobiernos estatales y plantear soluciones que garanticen la viabilidad del sistema para toda una generación esta reflexión es una de las notas destacadas

del colectivo sostiene que es factible un sistema de pensiones gestionado por la administración vasca y alimentado por las cotizaciones de los trabajadores vascos

en el otro plano el relativo a la calle y la sociedad

las pensiones bajas creemos en el sistema y no podemos ni dejamos a nadie atrás

ya estamos iniciando los contactos y otra cosa es ante la realidad y ante la situación jurídica en la que nos encontramos seguiremos atendiendo las necesidades que los pensionistas vascos y vascas tengan en relación al complemento en base

señora artolazabal tengo que decir que me ha sorprendido su respuesta

mucho que me haya dicho que está de acuerdo con muchas de las afirmaciones porque de eso se trata de que estemos de acuerdo

que es mucho más que el sistema de pensiones como usted bien ha dicho y nosotras en eh bildu lo tenemos clarísimo

no cejamos en el empeño porque creemos que para garantizar unas pensiones públicas dignas la herramienta es un sistema propio un sistema público de pensiones propio

y es así donde encuadramos los complementos de pensiones que usted

y lo respaldamos y los impulsamos y por eso hoy hemos planteado esta interpelación porque creemos que este gobierno tiene una obligación respecto a los pensionistas y tiene que responder a todos esos pensionistas que reclaman una pensión digna

y no puedo más que decirle que me sorprende su respuesta y su

posicionamiento respecto al sistema de pensiones y ya que me hable de las encuestas de los economistas ya me ha parecido absolutamente

porque no me sale otra palabra flipante después de la respuesta de la consejera san josé hace dos semanas claro hoy ya sí que ya no sé quién se encarga de cada cosa en este gobierno

me habla de la posible viabilidad del sistema de pensiones vasco

la consejera san josé dice que no es factible un sistema de pensiones vasco son ustedes miembros del mismo gobierno no sé algún día se tendrán que aclarar

vasco o no creen este gobierno en un sistema de pensiones vasco porque hace quince días la señora san josé dijo que no lo ha dicho en diferentes medios de comunicación

o sea ella habla del sistema de pensiones el complemento de pensiones lo tiene que tratar usted la negociación el señor que acaba de marchar bueno esto de verdad que uno no sabía muy bien

eso se dice en mi casa y eso es lo que está pasando en este gobierno eso es lo que estaba pasando en este gobierno que existe el complemento sí pero es que no puede ser solo eso y yo entiendo que es suficiente usted me ha lanzado lo del ocho por ciento

yo no voy a entrar ahí porque ya sabe el posicionamiento de mi grupo pero es que llevamos tenemos todavía un siete por ciento que rebajó todas las ayudas y usted lo sabe también como yo el gobierno de patxi lópez que el gobierno de urkullu mantuvo y en estos presupuestos siguen manteniéndose un siete por ciento

rebajas y recortes desde hace bastante tiempo respecto al complemento de pensiones que este gobierno está pagando gracias a una ley que se instaura en el dos mil ocho y que orgullosamente puedo decir

esa ley y la disposición transitoria que entra volveré a hablar de ella y otra vez entramos en una contradicción me la sé claro que me la sé

eso es lo que dice el estatuto no dice absolutamente nada de lo que su compañera

más de una vez ha dicho que es la unidad de caja la unidad de caja no aparece ni en el estatuto de autonomía

en ninguno de los dos es más aparece en una ley posterior con rango inferior a cualquiera de las dos tanto del estatuto

aclárense vamos a trabajar en este país porque todos los pensionistas de este país tengan una pensión digna sí o no vamos a trabajar por tener

como debe de ser correcta total absoluta haciendo las cosas como tienen que ser porque esa es la manera de garantizar que todos nuestros pensionistas tengan una vida digna sí o no porque al final si no estamos haciendo lo que usted me acaba de decir parches

parches y parches a un sistema el español que no da más de sí

no da más de sí no da más de sí y si está en revisión es porque no da más de sí y lamentablemente las medidas que se están poniendo encima de la mesa en esa revisión son alagar la edad de jubilación

sí o sí cada vez más pequeñas porque no va a dar para repartir más y encima alguno todavía tiene

una pensión privada porque claro la pensión pública no va a dar para todos esa es la situación que tenemos y esa es la situación que los pensionistas de este país no tienen por qué soportar porque hay camino por hacer

con el objetivo de mejorar la situación de las pensiones de los ciudadanos y ciudadanas vascas desde luego yo tengo una coordinación excelente con mi compañera la señora san josé y vamos a seguir trabajando como ella sí adelantó también ir avanzando en la transferencia de las competencias que

dicho esto y aunque considere usted que debemos ir más allá de la solicitud de la competencia

en ello sí que tengo que decirle que la situaciones

adecuada por parte de la renta de garantía de ingresos el lehendakari ya lo dijo en un pleno de control y se lo vuelvo a repetir y recordó que el estatuto contempla

de autonomía dentro del principio de una unidad de la seguridad social garantizando la solidaridad y suscribiendo convenios con los órganos estatales

y este traspaso puede compatibilizarse con el concierto económico

dentro de su carácter unitario y de respeto al principio de solidaridad y todo ello mediante un convenio tal y como establece la disposición transitoria quinta yo no he dicho nada

en su programa de gobierno considero sinceramente que desde el sistema de garantía de ingresos y de inclusión social dotamos de dignidad a las personas beneficiarias que este sistema hace ya una aportación a la justicia social a la cohesión a la integración al desarrollo humano y a los indicadores de una sociedad avanzada de incalculable valor y que no deja a nadie atrás

un sistema vasco de pensiones aportaría dignidad al actual sistema y sería coherente con el resto de sistemas que forman parte de los pilares de los derechos sociales en euskadi

actuamos con responsabilidad ante cuestiones de máximo calado no caigamos en el error de generar mensajes de miedo con una cuestión tan delicada

ya que no se considera el impacto de la productividad en el crecimiento de la riqueza

el porcentaje de la población que trabajaba en el campo en la producción de alimentos era del dieciocho por ciento hoy solo es el dos por ciento y ese dos por ciento más esas personas producen más de lo que producían el dieciocho por ciento hace cuarenta años imagínese la situación que en ese momento se le hubiera presentado a cualquier economista

como cada año hay menos trabajadores en el campo no se producirían suficientes alimentos y nos moriríamos de hambre

creo más que nunca que es el momento de aunar fuerzas y mensajes en la solicitud de la transferencia de las políticas pasivas de empleo y tal y como se consiguió en el año mil novecientos ochenta y nueve debemos conseguir un amplio consenso en la edificación

para la cohesión y justicia social y por último decirle que el gobierno vasco

que tenemos asumidas tiene un sistema de protección que palia

que los pensionistas vascos y vascas puedan tener nosotros estamos trabajando y vamos a seguir trabajando de una forma coordinada dentro del propio gobierno para que la transferencia dentro de lo que es el estatuto de gernika sea a lo largo de la legislatura

lanbide sigue siendo un problema lanbide no ha dejado de tener problemas lanbide ustedes lo han convertido en un problema lanbide

y el enfermo se está volviendo crónico este gobierno desde luego consideramos desde el grupo popular que no puede seguir impasible ante los casos de irregularidades fraude y abusos que día a día estamos conociendo tramas que falsifican pasaportes para estafar a lanbide

que son detenidos por tráfico de drogas yihadistas que siguen cobrando la

y están combatiendo yihadistas que ya han sido condenados por delitos de terrorismo

consejera es criterio de este gobierno seguir sin modificar la actual regulación

que está permitiendo todas estas situaciones que están generando una autentica alarma social eskerrik asko garrido andrea erantzuteko artolazabal andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar mahaiburu andrea señora garrido le recuerdo que la normativa que regula

se aprobó en el parlamento y lo hizo con el apoyo de su grupo

que nuestro grupo no apoyó esa normativa que lanbide ejecuta la regulación aprobada por la mayoría de esta cámara y en este caso la normativa se aprobó con el apoyo del partido popular de todas formas usted genera alarma social cree usted que genera alarma social el sistema de protección que atiende un total de ciento catorce mil cuatrocientos doce personas en riesgo de exclusión social

genera alarma social un sistema construido durante veintiocho años ante una situación y necesidad de muchas familias y personas con un consenso social y político amplio

una regulación que permite garantizar una vida digna a las personas pensionistas cuyas pensiones no llegan a cubrir sus necesidades básicas lo hemos comentado antes acaso genera alarma social genera alarma social la regulación de una ayuda que mantiene y permite que lleven una vida digna treinta y seis mil quinientos ochenta y tres familias que no disponen de ningún

con estas y otras medidas el crecimiento social y económico se está asentando las instituciones trabajamos para conseguir empleo de mayor calidad y crear nuevas oportunidades para la juventud

que no tengan recursos puedan salir adelante señora garrido la sociedad no va a permitir que se estigmatice y ponga en cuestión un sistema que hace que euskadi

con valores de los que estamos orgullosos y que son compartidos por la europa más avanzada eskerrik asko artolazabal andrea garrido andrea zurea da hitza

mire señora consejera lo que genera alarma social a la ciudadanía vasca es la inacción de un gobierno

día estamos conociendo cuatro años perdidos ustedes tienen ya el diagnóstico de la situación en todos los datos

desde luego no tenemos confianza en un gobierno que ni ha actuado ni actúa

que actúe nosotros aprobamos la ley del dos mil ocho también aprobamos unas modificaciones

también hace muchos años veníamos reclamando una unidad de control en el sistema de protección que se estableció al final fruto de la exigencia del partido popular y que se está demostrando que es absolutamente

que se cumplen los requisitos una vez que se está en el sistema desde luego no tenemos confianza en un gobierno cuando en el calendario legislativo la previsión

se sitúa en el segundo semestre del dos mil dieciocho cuatro años perdidos más dos años perdidos de momento señora consejera

tomado ustedes en consideración la ilp suscrita por más de cuarenta mil ciudadanos a los que ustedes dieron un sonoro portazo y silenciaron no se estarían produciendo situaciones como las que se están produciendo ahora

fue presentada como proposición de ley por el partido popular se contemplaba expresamente que aquellas personas que tuvieran por ejemplo delitos

delitos contra la salud pública delitos contra el terrorismo es decir los requisitos

el debate en dos ocasiones sabe cuál fue el argumento en esa ocasión que no había un periodo estable de implantación suficiente para ver la evaluación de las medidas adoptadas los controles están fallando y están fallando de forma clamorosa señora consejera cómo puede ser que alguien siga cobrando la rgi

no me diga que los controles están funcionando no me dirá que esa unidad de control es suficiente la percepción es que lanbide es un absoluto coladero

hace mucho tiempo este gobierno tenía que haber pasado a la acción porque ustedes ya tenían un diagnóstico porque el señor toña ya decía que había un informe

dilatorias y ya vale de que nos tomen el pelo y que cojan de una vez por todas al toro por los cuernos eskerrik asko garrido andrea artolazabal andrea zurea da hitza

tan serias como esta a nadie yo soy consejera desde hace tres meses creo que

hemos dado pasos importantes y vamos a dar más pasos importantes con el objetivo de que esta situación

me preocupa tanto como a usted o más se corrija y se subsane creo que están poniendo el foco en

que flaco favor están haciendo a lo que es lanbide y a lo que es el sistema de protección que en este país

creo que ustedes están poniendo deliberadamente el foco en situaciones que están

perjudicando a todo un modelo que nosotros como país nos hemos dotado

y no trasladen datos puntuales y aislados que desvirtúan el objetivo de la incorporación de personas que están en situaciones muy complicadas al mercado laboral y también a su contribución a la sociedad se han realizado desde el año dos mil doce

en la comparecencia y también se lo reconocí en la presentación de presupuestos y estamos avanzando primero en lo que tiene que ser la reforma integral

en cuestiones de protocolos internos que en lanbide en breves fechas vamos a modificar

que se han producido intercambios de datos bien con las administraciones vascas bien con la administración española también me gustaría que nos ayudara a la hora de que la ministra de empleo y trabajo nos proporcionara la interoperabilidad a la hora de compaginar los datos lanbide no es una policía lanbide no tiene los datos de los terroristas lanbide cuando la gente se presenta en nuestras oficinas no les dice si tiene intención de atentar

cuando se presenta en esas oficinas y se les da una prestación en base a las situaciones que tienen en ese momento

río zadorra es un cauce que sufre fuertes alteraciones en su caudal debido a los embalses

tiene un caudal mínimo en época de desembalses de emergencia

suelen provocar graves inundaciones en el entorno de la capital en octubre de dos mil doce el ayuntamiento de vitoria gasteiz y la agencia vasca del agua firmaron un acuerdo

en el término municipal a lo largo del periodo dos mil trece dos mil veinte a pesar de dicho acuerdo la inversión de ura

octubre de dos mil doce se firmó además un convenio para la ejecución de la fase dos de ese acuerdo marco

hemos comprobado que una vez más en el presupuesto de dos mil diecisiete no se destina ninguna partida económica

previstas en el convenio que firmaron el ayuntamiento de vitoria gasteiz y la agencia vasca del agua en octubre de dos mil doce se están acometiendo por fases

la cláusula tercera de dicho convenio establece que el importe previsto como aportación máxima de ura para la redacción y ejecución

esta fase dos como usted recordaba aquí es de dos millónes treinta mil euros desde la firma del convenio se han avanzado dos actuaciones

la primera es la ampliación de la pasarela peatonal de abetxuko realizada entre los años dos mil trece y dos mil catorce con un presupuesto ejecutado de setecientos treinta y uno mil setecientos veinticinco euros y la segunda de ellas

que se está ejecutando a lo largo del pasado año y de este ejercicio dos mil diecisiete pero el proyecto de presupuesto del presente ejercicio dos mil diecisiete se ha previsto una partida de ochenta y tres mil seiscientos veintitrés euros con la que se cubrirá el coste final

el resto de actuaciones de la segunda fase que usted mencionaba se contemplan en un proyecto acordado en dos mil dieciséis entre el ayuntamiento de vitoria gasteiz y ura

asciende a dos coma seis millónes de euros es decir el coste de las actuaciones de la fase segunda va a suponer una cuantía cercana a los cuatro millónes de euros lo que excede claramente del compromiso previsto por ura en el convenio firmado con el ayuntamiento de vitoria gasteiz en el año

señor arriola le agradezco las explicaciones pero creo que

van dirigidas a mezclar actuaciones las actuaciones sobre el puente abetxuko no estaban incluidas en esa fase dos por lo tanto todo ese coste que posiblemente

que por lo que yo sé no se ha acometido y era la principal actuación destinada

entiendo que los costes ahora mismo de las actuaciones de planificación hidráulica son en ocasiones difícilmente asumibles en la situación en que han dejado el presupuesto de su departamento

la primera es que los convenios cuando se firman es para cumplirlos y en este caso un convenio de dos mil doce que está en vigor y que no ha sido objeto de cuestionamiento

debe ser cumplido sí o sí entiendo que eso es así la segunda cuestión es la que hace referencia a con qué criterio reparten ustedes los fondos disponibles los escasos fondo disponibles me atrevería a decir en materia de planificación hidráulica

que la forma de repartirlos la forma más objetiva es atender al criterio de cumplir aquello que ya se ha firmado de forma preferente entonces

a los presupuestos que han presentado ustedes en materia de prevención de inundaciones nos encontramos con un montón de partidas de las cuales en el territorio de araba solamente se destina

no me gustaría hacer victimismos con esta cuestión pero sí entiendo que en el caso particular

habría que hacer referencia a que habiendo un convenio que es de obligado cumplimiento debería haber sido una cuestión prioritaria y cinco años después estamos sin que se esté cumpliendo
en toda su plenitud muchas gracias eskerrik asko becerra jauna arriola jauna zurea da hitza

y probablemente el puente de abetxuko originalmente en octubre de dos mil doce no iba a ser objeto de desarrollo en la fase dos probablemente iba a desaparecer

esa cuestión y proceder a la rehabilitación del puente de abetxuko que además es una obra que está quedando muy bien desde el punto de vista hidráulico y también de protección

que se pone en valor con la actuación por parte de la agencia vasca del agua el proyecto al que he hecho referencia es un proyecto acordado entre ura y el ayuntamiento de vitoria en dos mil dieciséis es un proyecto que en estos momentos

y que va a avanzar también en su tramitación ambiental estamos en las fechas que estamos y teniendo en cuenta esta situación difícilmente podríamos iniciar las obras

podríamos iniciar el proceso de licitación de estas obras en el último trimestre de este año

aunque sean heredados de cara a futuro también

que voy a intentar que lo que se comprometa sea en función de las capacidades reales presupuestarias en cada momento es verdad que las disponibilidades presupuestarias de la agencia vasco del agua no son las que fueron en otros tiempos

en este asunto en concreto nuestra previsión es que estas obras puedan acometerse y financiarse mediante un gasto plurianual entre los años

y dos mil diecinueve eskerrik asko arriola jauna

gracias señora presidenta buenos días señorías señor consejero a mediados del mes de diciembre pasado dos mil dieciséis

que ha desarrollado y desarrolla una prolija actividad laboral en múltiples empresas que pueden tener una directa incidencia en las actuaciones

en especial lo relacionado con lo que se dispone en la ley uno barra dos mil catorce

y de los conflictos de intereses de los cargos públicos y el código de conducta del gobierno vasco recordar que ura agencia vasca del agua tiene como funciones principalmente

la persona nombrada por usted para este cargo ha ocupado treinta y dos cargos en veinticinco sociedades de los que doce cargos están vigentes actualmente en el registro mercantil señor consejero

de la agencia vasca del agua en contra del marco ético legal y vigente eskerrik asko lópez de ocariz andrea arriola jauna zurea da hitza

gracias presidenta señora lópez de ocariz me pregunta su señoría si es mi criterio mantener en su puesto al director general de la agencia vasca del agua ura

sí porque esta persona reúne sobradamente las condiciones técnicas y profesionales para desempeñar este cargo y además porque

que contradiga el código ético y de conducta de los cargos públicos de este gobierno eskerrik asko arriola jauna lópez de ocariz andrea zurea da hitza

señor consejero usted sabe que se sustanció en esta cámara la comparecencia de esta persona que está claro que hay un conflicto de intereses

anterior porque e señor director de la agencia vasca del agua no reconoció que tiene actualmente vigentes doce cargos activos en diez empresas y ute y que en su actividad anterior tuvo relación con muchas más empresas que las dos que él citó y nos preguntamos si no recuerda que ha tenido y tiene relación con veinticinco sociedades

a hacer esta persona según la ley reguladora del código de conducta y conflicto de intereses del cargo público como dice el artículo diez punto tres de esta ley

el adecuado control si el cargo interesado dice no recordar más actividades previas que dos

señor consejero según la ley es el registro de personal la sección de actividades quien debe actuar porque señorías señor consejero según el artículo veintiocho

de sanciones la presentación de declaraciones con datos o documentos falsos el incumplimiento grave

infracción grave o muy grave y puede llegar a ser sancionada incluso con la destitución por lo tanto

imprescindible aclarar estas cuestiones y que la declaración se ajuste a la realidad porque la comparecencia de esta persona en la comisión nadie tiene que ver con la realidad señor

uno barra dos mil catorce y dice expresamente que los cargos públicos especialmente en los casos en los que ocupen una posición prevalente en el gobierno ejemplo que

tanto la ciudadanía como el resto de personas que trabajan en la entidad pública por lo que deben de evitar cualquier acción u omisión que perjudique siquiera

o la imagen institucional de la administración del gobierno vasco evitando así minar la confianza que la ciudadanía tiene en su sistema institucional

y los principios que rigen van dirigidos expresamente a respetar los principios de imparcialidad ecuanimidad y objetividad alguien que no reconoce la actividad que ha desarrollado

cómo va a ejercer esa ecuanimidad cuándo se va a abstener en qué condiciones

señor consejero creo que esto requiere de alguna modificación no le parece eskerrik asko lópez de ocariz andrea arriola jauna zurea da hitza

señora lópez de ocariz vayamos a los hechos y no al perjuicio

es un ingeniero con una trayectoria profesional muy destacada

en puestos de responsabilidad en una importante empresa constructora vasca

es por lo que le propuse acceder al puesto de director de ura para que la administración vasca pudiera valerse

acumulada en el sector privado el consejo de gobierno

el dieciséis de diciembre para entonces ya estaba desvinculado evidentemente

ha tenido participación accionarial y estaba desvinculado también de todos los consejos de administración

de esa antigua empresa es decir antes de ser nombrado ya dejó de ejercer responsabilidades de representación

había asumido en otras sociedades a partir de entonces

con todos los requisitos exigibles al cargo público que ocupa el cuatro de enero firmó la declaración de adhesión el código ético y de conducta del gobierno el diecisiete de enero formalizó la declaración de actividades autorizando expresamente al servicio de registro de personal

con la declaración de bienes y derechos patrimoniales usted se aferra a una cuestión

que como bien sabe lleva su tiempo lo cierto es que esta persona

en ningún momento ningún acto reprochable ninguno sino que ha atendido todas las obligaciones éticas exigidas

es más al enterarse de que no se le había dado de baja en algunos consejos de administración una acción que correspondía a su antigua empresa el señor martínez de cabredo envió a esas sociedades

solicitando que quedara constancia de tal hecho de modo que si

es de conducirse en todo momento de buena fe y en modo alguno se le puede acusar de ocultamiento o de haber actuado

ilegal vigente y como dato adicional

informarle que en estricto cumplimiento del código ético

el director de ura comunicó al registro de personal su inhibición y exención en el concurso

decisión que me trasladó también a mí como no podía ser de otra manera muchas gracias

hori aintzat kontutan hartuta jarraitzen dugu eraikitzen tenemos una sociedad bien formada gracias a ello y las generaciones actuales también lo están siendo y lo serán en el futuro

tales como las realizadas en torno al bilingüismo y el plurilingüismo las tecnologías de la información y la comunicación la atención a la diversidad o a la convivencia

la investigación educativa está contribuyendo más que nunca estos últimos años con propuestas y alternativas para la intervención con el alumnado

para ello nuestra propuesta para lograr una educación integral a través del desarrollo de competencias

es una apuesta que guía todos los proyectos que se ponen en marcha con la finalidad de mejorar la situación de la educación en el país vasco hemos trabajando intensamente de la mano de los agentes educativos y así lo vamos a seguir haciendo

el modelo educativo fue elaborado con la participación de los agentes educativos los decretos curriculares por primera vez elaborados con las aportaciones de todos los agentes siendo competencia del gobierno es el camino

y ahora corresponde la implementación el desarrollo a través de las distintas líneas estratégicas y a partir de los compromisos adquiridos

el aprendizaje por competencias supone activar nuevas formas de intervenir con el alumnado para que vaya desarrollando habilidades a través de procedimientos y estrategias que le permitan dar una respuesta adecuada ante determinadas situaciones que superan un binomio previamente establecido

o dicho de otra forma sin que la evaluación forme parte de la situación de aprendizaje

un sistema de evaluación acordado tal y como he manifestado anteriormente un sistema de evaluación cuyo objetivo sea la mejora

del centro educativo a través de los planes de mejora y del sistema educativo vasco en general a través de la planificación las líneas estratégicas y la formación del profesorado usted en su petición

en mi intervención de presentación del informe pisa bai idatzita dago zure eskaeran

detallé algunas de las principales iniciativas a llevar a cabo con estos tres objetivos estratégicos el aula la compresión lectora y la formación del profesorado

de enseñanza entre las iniciativas señalaba la necesidad de ofrecer herramientas para hacer llegar al aula la enseñanza por competencias para lo cual debe priorizarse la formación de los docentes reorientando su formación y conocimientos a los cambios que se están produciendo en la educación a nivel mundial entre otras

sin embargo los partidos de la oposición y algunos sindicatos han manifestado que estas medidas suponen un ataque frontal al profesorado nada más lejos de mi intervención todo lo contrario

que tenemos unos muy buenos profesionales y que es responsabilidad del gobierno vasco poner a su disposición las herramientas necesarias

para su formación inicial y continua pero lo que me llena de preocupación es que se consiga confundir a la ciudadanía desde el gobierno vasco asumimos nuestra responsabilidad en ello pero creo sinceramente que es función de toda la sociedad implicarse en ese objetivo es labor de la administración

y en general de todos los integrantes de la comunidad educativa de los agentes sociales y políticos cada uno desde su ámbito

por otro lado usted habla también del proyecto de presupuesto continuista yo le digo que es un proyecto

y acorde con el programa planteado que da respuesta a los compromisos adquiridos y las necesidades de mejora que se van planteando acorde con la implementación necesaria de modelo educativo

las situaciones de aprendizaje en este nuevo paradigma conciben la educación como respuesta a los diferentes ritmos necesidades y diferencias de nuestro alumnado configurando un marco en el que se reconoce y valora la diversidad porque enriquece a todo el alumnado sin excepción en este sentido lejos de impulsar una educación

estamos trabajando por la equidad y la excelencia en nuestro sistema educativo entendiendo que este es el camino para contribuir a la construcción de una sociedad competente para responder a los diferentes retos que se nos plantean

en relación a otras cuestiones como jubilaciones régimen de sustituciones ope tasas de reposición etcétera cabe recordar que en nuestra toma de decisiones estamos a una normativa básica estatal limitativa que este gobierno

normativa propia y por ello viene trabajando día a día y reclamando cuando tiene ocasión

saben bien de la defensa que la administración vasca ha hecho por el mantenimiento de la jornada semanal

logrando en consecuencia el mantenimiento de las plantillas docentes y la cobertura de todas las necesidades quiero subrayar de nuevo en relación al profesorado que es a mi juicio el principal agente de cambio y el éxito educativo de nuestro alumnado y ahí precisamente y por esa razón queremos incidir es uno de nuestros compromisos eso es lo que dije y lo que quise transmitir en mi comparecencia parlamentaria sobre pisa que tan manipulada ha estado centrar nuestros esfuerzos en la mejora de la función docente

es una de las decisiones estratégicas que debemos tomar de cara a una excelente educación de nuestros escolares todo ello redundará además en el crecimiento de la autoestima del reconocimiento del profesorado

y es que sinceramente no es así de hecho señora ubera en lo que llevamos de legislatura son dos las mesas sectoriales que se han desarrollando en estos tres meses y como conocen se ha desarrollado en el marco de la ope bi mila hamazazpi pero además

en las que en alguna ocasión y algunos sindicatos han optado por no asistir benetan diot

señorías señoras y señores consejeros buenos días

drogas fundamentalmente los jóvenes cada vez además es más temprana la edad de inicio en el consumo y gobierno vasco como gobiernos de otras comunidades autónomas han suscrito convenios para recibir fondos estatales para programas precisamente para combatir el consumo de drogas y el consumo de alcohol

diecisiete barra dos mil tres se han asignado al país vasco subvenciones para el desarrollo de planes

euros qué pasa en dos mil dieciséis lamentablemente el convenio de fondos decomisados

de tiempo suponemos que será un error

y que lo reconocerá y por eso décimos por qué razón el gobierno no formalizó el convenio referido fondos importantes para programas y planes de actuación sobre droga y consumo de alcohol en menores yo solamente quiero recordar el convenio suscrito en dos mil quince que hablaba de programa de intervención en toxicomanías en el centro penitenciario arabaálava

programa de prevención selectiva de centros educativos de la comunidad autónoma del país vasco

no fue formalizado este convenio en dos mil dieciséis eskerrik asko barrio jauna erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

zuen iaz ere ez zuen ordea horrelakorik egin ministerioak el gobierno vasco no tiene ningún inconveniente como ha pasado los años anteriores para tramitar este convenio el convenio sobre bienes decomisados

lo tramitó exactamente igual que los años precedentes como cada año una vez realizado los trámites

el pasado cuatro de octubre el documento fue remitido el catorce de octubre para la firma al ministerio de sanidad servicios sociales e igualdad sin embargo el documento nos fue devuelto por el ministerio sin firmar y voy a leer textualmente

el día diecinueve de octubre del dos mil dieciséis habiéndose cerrado el presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias por orden del catorce de julio por tanto señor barrio no es que el convenio del colaboración para el desarrollo

drogodependencias no quisiéramos firmar ni tampoco es que se firmara por falta de tiempo es que el gobierno de españa decidió cerrar el ejercicio presupuestario en julio en vez de hacerlo en noviembre como había sido habitual insisto

y dejó escaso margen de maniobra para su correcta tramitación eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna barrio jauna zurea da hitza

gracias señora presidenta con otras palabras el gobierno reconoce el error por qué

dieciocho comunidades autónomas es decir las otras dieciséis más ceuta y melilla cumplieron el plazo y firmaron el convenio

menos el país vasco junto ceuta y melilla firmaron todas el convenio el que incurrió en un defecto en un error fue el gobierno vasco presentando la documentación fuera de plazo

trescientos cincuenta y cuatro mil euros exactamente para ver lo que se ha podido trabajar en materia de programas de prevención de actuación en materia

eso es lo que se ha perdido y entonces hemos ido al presupuesto y hemos dicho bueno el gobierno vasco

por sus errores por no haber atendido al plazo establecido en relación con la firma de esos convenios

de percibir esas ayudas y además se reduce el presupuesto de adicciones

se aumentaba el presupuesto en salud pero se reduce el presupuesto en adicciones

algo ha fallado porque hemos dejado de percibir esa cantidad y además se vende incremento en relación con los programas de salud de su departamento sin embargo en adicciones baja

legislatura y este año iba a ser muy importante en relación con los programas normales ayudas a los ayuntamientos los programas de reducción de riesgos hablamos el otro día con la señora directora de salud pública de alcohol y menores el desarrollo de la ley de adicciones

además de dejar de percibir fondos a los que teníamos derecho por incapacidad del gobierno o por error del gobierno además bajamos de una manera cualitativa

como todos los años y en fechas similares si el gobierno de españa decidiera este año que cierra el ejercicio presupuestario en marzo seguramente volveremos a quedarnos sin tramitar mire le voy a dar las fechas

el quince de enero de dos mil dieciséis se nos remitió desde el plan nacional de drogas la documentación relativa al convenio dos mil dieciséis

remitimos a madrid los programas propuestos por la dirección de salud pública y adicciones para el citado convenio

cuatro meses después el ministerio nos remite el borrador del convenio el veinte de julio veintiuno días después devolvemos el borrador del convenio al ministerio de sanidad indicando nuestra conformidad y explicando

como todos los convenios tiene que pasar por el consejo de gobierno sin embargo no sirvió de nada puesto que el ministerio había cerrado el ejercicio presupuestario

el catorce de julio es más a mayor demanda nos remiten una llamada de teléfono el viernes veintidós de julio a las dos de la tarde indicando que excepcionalmente

el convenio el veinticinco de julio lunes santiago festivo en el ministerio por lo tanto efectivamente nos dieron cuatro días en la última semana del mes de julio para tramitar y pasar por el gobierno en todo caso señor barrio

actuó con seriedad y puede estar usted seguro que los planes de actuación previstos en relación al consumo de alcohol y drogas

con toda normalidad nada más recordar que el departamento de salud destinó dos coma seis millónes de euros en ayudas para el desarrollo de distintas actuaciones

y promoción de salud esperemos que este año el ministerio actúe con más diligencia y respete el cierre presupuestario y las fechas habituales eskerrik asko

compañeros y compañeras parlamentarios antes de empezar una vez más quiero mostrar mi solidaridad humana y política

de los seis trabajadores asesinados el tres de marzo del mil novecientos setenta y seis compañeros y compañeras que me han precedido ya lo han dicho

en aquella manifestación donde las fuerzas de seguridad dispararon

me han pedido que lo haga y lo hago con mucho gusto la pregunta que me anima

aquí son algunos problemas que están surgiendo en el hospital de urduliz

extraordinario humanista y republicano exconsejero del primer gobierno del lehendakari aguirre

el siete de julio ya estaban las consultas externas y la radiología en funcionamiento

va a tener ciento cuarenta y ocho camas seiscientos trabajadores y profesionales servicios de urgencia de rehabilitación de salud mental de imagen ocho quirófanos ciento cuarenta y ocho camas me parece consejero

un orgullo para los que defendemos el sistema público vasco un excelente hospital presupuestado

de gestión pública y de titularidad pública como bien se dice muy pocos hospitales en el estado español se han inaugurado con estas características un orgullo como solemos decir alguna gente de osakidetza cuando las cosas van bien osakidetza siempre en la brecha

uribe alguien del departamento de salud considera

externalizar como se dice ahora externalizar es privatizar aunque la campaña de comunicación en los medios de comunicación

mezclando las cosas y dicen palabras que no explican bien dar dinero del presupuesto público al sector privado es privatizar usted lo puede mirar como quiera como si lo quiere llamar pamplona

que piensa que es más ágil más rápido

no hay atajos para la gestión eficiente y se ha puesto en una carrera desenfrenada de privatizaciones

que ya en el mismo enero se pusieron en marcha nuestra pregunta es muy sencilla por qué señor consejero se ha puesto a privatizar

que ha ocasionado que todas las fuerzas sindicales fíjese que es difícil que se pongan de acuerdo las fuerzas sindicales todas están en contra

ayuntamientos plataformas ciudadanas están desdibujando una excelente iniciativa del departamento que es la inauguración

igual en la comisión de salud preparamos una visita si usted nos da permiso para ver

lo que pasa que es una situación inverosímil yo por ahora le hago estas preguntas por qué
esta modernez de las privatizaciones eskerrik asko uria jauna denbora agortu zaizu

una estructura nueva moderna y funcional

metros cuadrados y una inversión de sesenta millónes de euros con seiscientos profesionales que van a trabajar en ella pues es un aspecto importante

el pasado cuatro de julio del año pasado invitamos a la comisión de salud pero no tendremos ningún inconveniente

a visitarlo el hospital va a dar servicio a ciento setenta y cinco mil vecinos y vecinas y quiero no equivocarme al afirmar

y sinceramente no recibimos preocupación alguna respecto a si los servicios de lencería limpieza cocina cafetería vayan a ser ofrecidos por empresas especializadas o tenga que ser atendido por personal funcionario

le tengo que corregir porque no todos los sindicatos lo han criticado repase usted los sindicatos presentes y representados en la mesa sectorial

pero es importante poner de manifiesto la opinión de los y las pacientes como usted conoce

preguntamos por los servicios de restauración y limpieza pues bien el resultado es que estos servicios son valorados positivamente por el noventa y cinco por ciento

sin que exista ninguna diferencia en la valoración de estos servicios cuando se prestan por personal propio o se prestan mediante empresas especializadas realmente usted con el conocimiento sanitario que tiene cree que es lógico que un centro sanitario en el siglo veintiuno

cuando hay empresas especializadas que lo realizan con eficiencia y profesionalidad

la legislatura anterior en lo que le conozco estoy seguro que usted no está incomodo como parlamentario vasco porque esta cámara tenga externalizado el servicio de limpieza o porque la cafetería de esta cámara el parlamento se gestione por una empresa especializada entiendo que no cuántos de los ayuntamientos que gobernamos todos los grupos políticos incluidos ustedes en españa

creo sinceramente que se está intentando alimentar un debate que no existe en la sociedad la sociedad lo que quiere es contar con un sistema

eficiente y adecuado a sus necesidades de salud en mi opinión nuestra decisión de externalizar exclusivamente los servicios de cocina

cafetería lencería y limpieza que están externalizados como usted bien sabe en todos los hospitales

es una decisión acertada dado que este modelo de gestión ha demostrado sobradamente su eficiencia y la calidad del servicio

público que mayoritariamente está centrado como debe ser en el ámbito asistencial donde concentra la mayor parte de sus trabajadores y sus recursos económicos y que utilizamos la gestión externa para algunas áreas complementarias

a la memoria y a la reivindicación respecto a las víctimas del tres de marzo y al también trabajador vicente antón ferrero asesinado también unos días después en aquel trágico año mi pregunta formalmente se la hago a usted señora san josé es una pregunta para el conjunto del gobierno como ustedes saben antes de ayer hubo una huelga convocada por las y los trabajadores de la empresa pública euskotren una huelga de veinticuatro horas

con ellos en las puertas del juzgado de donostia porque la huelga estaba convocada a raíz de una demanda que la empresa pública euskotren ha realizado a representantes de los trabajadores

por una convocatoria de huelga que hicieron y que finalmente no se llevó a cabo por lo tanto consideramos que

absurda porque aquella huelga no se llegó a realizar y sin embargo la empresa decidió seguir adelante ataque contra los trabajadores entonces nosotros la pregunta es si el gobierno está de acuerdo con estas acciones de la empresa puesto que el conjunto de trabajadores y el comité de empresa han denunciado que hay una estrategia de la empresa para recortar derechos de los trabajadores y para atacar sus derechos legítimos de huelga eskerrik asko

acerca del proceso judicial emprendido por una empresa pública dependiente del gobierno vasco

voy a comenzar por contextualizar el asunto que nos trae usted a este pleno en diferentes días de octubre y noviembre del dos mil dieciséis se convocó por parte del sindicato lab y otros representantes sindicales independientes de la empresa pública euskotren una huelga para tratar de hacer fuerza y conseguir sus reivindicaciones como usted bien sabe el recurso de la huelga se utiliza cuando se ha roto la negociación

es un recurso legítimo y legal y sobre el que se regulan diversos aspectos la propia legalidad o no de una convocatoria de huelga determinada el establecimiento de servicios mínimos

que esa determinada huelga tiene el carácter de abusiva toda esta casuística provoca que al conflicto ya generado entre las partes se pueda añadir demanda ante los tribunales

el derecho a la huelga o porque consideran que los servicios mínimos establecidos son excesivos otras veces son las empresas las que estiman que la huelga convocada es ilegal por su objetivo en otras ocasiones las empresas como es el caso por el que me pregunta señor hernández

equilibrados los distintos derechos que colisionan la huelga convocada en euskotren se presentó con un desarrollo basado en paros

un patrón de intermitencia establecido en función de las fechas afectadas

su dirección consideró que el planteamiento que hicieron los convocantes para el desarrollo de la huelga le confería el carácter de huelga abusiva esta es la razón aducida por la empresa al interponer demanda ante los juzgados

el desarrollo previsto para esta en concreto perjudicaba gravemente el servicio a los usuarios y es por ello por lo que se considera oportuno

hay sentencias del tribunal constitucional por ejemplo sobre este aspecto que remiten a los tribunales de justicia ordinarios para que sean ellos quienes dictaminen ante esta situación la opinión de esta consejera como competente del gobierno vasco en materia de relaciones laborales

las partes en conflicto y dado que una de ellas ha considerado oportuno llevar el asunto a los tribunales esperar a que estos se pronuncien eskerrik asko eskerrik asko

yo no le he preguntado por los argumentos de la empresa yo ya conozco los argumentos de la empresa para denunciar a estos representantes de los trabajadores yo

y entiendo que la respuesta es que sí le pregunto si este gobierno respalda la actitud de la empresa a la hora de denunciar a estos representantes legales de los trabajadores sobre todo por una cuestión porque les está denunciando por una huelga que finalmente no realizaron y por lo tanto

grave que en una empresa pública además que nosotros consideramos que tiene que dar ejemplo en cuanto a las relaciones con los trabajadores se siga adelante con una denuncia

a realizar otra huelga antes de ayer nos preocupa y nos preocupa además que la empresa ha utilizado esta demanda como chantaje hacía los trabajadores porque

les propuso retirar la demanda si retiraban otra serie de convocatorias de paros que habían hecho parte de la representación sindical y a nosotros nos parece

hacia los trabajadores y este conflicto en el que se ha metido

que haya ahora muy pocos representantes del gobierno porque detrás de la empresa entiendo que está el gobierno vasco

en el que no hacía falta meterse porque como la propia empresa reconoce en otros aspectos llegan a acuerdos y nos preocupa porque estamos viendo que no es una invención nuestra aunque aquí se diga que las relaciones con los trabajadores públicos por parte de este gobierno la semana pasada pudimos comprobarlo todos los sindicatos y aquí digo todos los sindicatos porque estábamos presentes estuvieron en la comisión de gobernanza pública

de este gobierno con respecto a los trabajadores públicos es nula que es una actitud nula para la negociación que es una actitud de desprecio

la calidad en el trabajo los derechos en el trabajo de los trabajadores es fundamental y va a ser fundamental a nosotros nos cuesta creer que esto vaya a ser así cuando

difícilmente va a poder hacerlo este gobierno defender los derechos de los trabajadores en las empresas privadas por eso nos preocupa que el conflicto de euskotren evidencia
la actitud del gobierno con respecto a los trabajadores eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna san josé andrea zurea da hitza

está la de velar por el desarrollo armónico de las relaciones laborales entre los agentes sociales de nuestra comunidad le puedo asegurar que para el departamento que dirijo la convocatoria de cualquier huelga es una preocupación y si esta se desarrolla en una empresa que presta un servicio público como es el transporte de personas procuramos hacer todo lo que está a nuestro alcance para mediar para que las partes acerquen posturas

al respeto al derecho a la huelga que ejercitan los trabajadores y como no podía ser otra manera también a las resoluciones judiciales eskerrik asko

de lo que plantea en la justificación de su pregunta la relevancia de la investigación y del colectivo que la desarrolla

la mayoría de la universidad pública vasca pero también en otros treinta y seis centros universitarios españoles internacionales le aseguro que es de interés del gobierno vasco que se mantengan los contratos de los investigadores y que sea en las mejores condiciones laborales posibles en áreas de la eficiencia y eficacia voy a centrarme en la situación del colectivo al que se refiere y si efectivamente son necesarias fórmulas para resolver un conflicto en el caso de que lo hubiere

de la ley de la ciencia la tecnología y la innovación en ellos se dice expresamente que las personas que sean contratadas con este sistema podrán serlo por un periodo no inferior a un año y superior a cuatro y

para las que el tiempo máximo del contrato no podrá ser superior a seis años estamos hablando por tanto de unos contratos de carácter especial cuyas condiciones no están limitadas por el código en el que

del contrato por lo tanto los derechos a los que se pueden acoger los firmantes de los mismos no están supeditados por la modalidad de los contratos laborales en prácticas sino por la modalidad elegida a la hora de formalizar el contrato extremo

citada ley anterior por lo tanto cuestiones como la tarjeta sanitaria indemnización posibles nuevos contratos y otras no están sujetas a lo que determinan los contratos en prácticas nuestra conclusión es que las personas que han firmado estos contratos tienen sus derechos

por parte del gobierno vasco vamos a defender que al colectivo de personas investigadoras les sean garantizados sus derechos conscientes de que en caso

serán los tribunales quienes tengan que dictar sentencia sobre el derecho a indemnización u otras condiciones puedo asegurarle que desde el departamento competente como es el de educación se están realizando las

para conocer las repercusiones que pueda haber en los contratos realizados por las personas beneficiarias de las ayudas del gobierno vasco eskerrik asko san josé andrea casanova jauna zurea da hitza

tenemos muy poco tiempo para una discusión que puede llegar a ser compleja pero deduzco de su respuesta

que no ha pasado nada pues lógicamente seguirán observando atentamente pero ni han estado ni se les espera por lo visto al lado de estas personas hay

y las cifras que ellos dan son quinientos y pico en la upv y más de sesenta en la universidad de deusto por tanto yo sigo manteniendo esa cifra de seiscientos pero independientemente de que sea un tema complejo y que pueda tener diferentes interpretaciones lo cierto es que se ha tomado una medida no se haya acordado con el colectivo afectado es que ni se ha negociado ni se les ha informado se han tenido que enterar a través de terceros de que realmente se les había cambiado la modalidad de contratación

la ciencia la tecnología los investigadores la industria avanzada que bastantes problemas tienen con su propio trabajo

para que no se les maree más con este tipo de cambios unilaterales por tanto

propia conferencia de rectores ha cambiado de parecer ayer mismo
pero ustedes desde luego parece que no tiene intención de hacer nada por tanto cuando se resuelve les podrán casanova jauna bukatu da zure denbora

señor casanova en mi primera intervención he tratado de explicarle cuál es la situación de los contratados predoctorales cuáles son sus derechos y nuestra

usted afirma que la decisión unilateral del gobierno del estado ha perjudicado a nuestros investigadores en primer lugar le digo que ni a mí

nos ha parecido correcta la decisión adoptada y sobre todo que no nos haya sido notificada pensamos que una decisión que afecta a personas beneficiarias de ayudas gobierno debería ser previamente

los compromisos que tenemos con el programa y el colectivo pero también tengo que decirle que legalmente las modificaciones efectuadas en los códigos de registro en la tesorería

general de la seguridad social no deben afectar a los derechos contraídos por el contrato laboral eskerrik asko

sahara herriaren onespenik gabe por ello el parlamento vasco uno llama a que se respete y cumpla la sentencia del tribunal de justicia de la unión europea de veintiuno de diciembre del dos mil dieciséis donde se establece que los acuerdos de asociación y liberalización